consejeros parlamentarias y parlamentarios como nos ha dicho la señora ubera es verdad que ha venido

este tema a este parlamento yo me incorporé a la decisión primavera tardía del año diecisiete donde tratamos el tema y lo aprobamos por unanimidad en otoño del diecisiete en noviembre

y si bien no conseguimos la unanimidad sí salió por mayoría la voluntad común de articular de una vez

el transporte escolar y aquí estamos casi un año después tenemos un instrumento que es el decreto sesenta y nueve del dos mil quince

en una presunta burocracia excesiva o en una presunta dejadez de la consejería estamos obligados a ser exigentes como

pero eso no nos obliga ni por supuesto nos permite a ser injustos qué sabemos de este tema la consejera tuvo la amabilidad de informarnos a mí personalmente y sabemos que el tema de los niños de dos años es un tema que preocupa gravemente a la consejería sabemos que se están dando pasos sabemos que es un problema más o menos

que es que la decisión de proveer de la mayor seguridad a los niños de dos años pueda materialmente llevarse a cabo lo sabemos entonces creemos que este tema está en vías de solución pero nuestra labor es ser exigentes

pero luego tenemos otro problema que a nuestro grupo le preocupa grandemente que es el problema de los jóvenes

eskerrik asko es el problema de los jóvenes de dieciséis a dieciocho años que han terminado la enseñanza obligatoria y que sobre todo en álava necesitan trasladarse para seguir estudiando no les voy a dar los datos otra vez porque sería repetitivo

de hace un año pero sí les voy a recordar algunas cosas

el territorio más grande el territorio más despoblado pero no solo despoblado en números absolutos sobre todo despoblado en números relativos porque el setenta y cinco por ciento

se concentra en vitoria y solo el veinticinco por ciento se reparte por el resto del territorio que es el territorio más grande de nuestra comunidad autónoma

nosotros creemos que conseguir que álava no se despueble

conseguir ávila perdón álava no se despueble bueno ávila tampoco ojalá pudiéramos conseguir pero conseguir que álava no se despueble

de país una política de país una política que implicara a todos los estamentos y a todas las administraciones entendemos que la consejería dirá bueno pero no es enseñanza obligatoria por qué me tienen que caer perdonen que lo diga coloquialmente todos los marrones estoy obligada con la enseñanza obligatoria no con la no obligatoria pero vamos a ver creemos verdaderamente que nuestros jóvenes

están preparados para salir al mundo laboral sin más armas o creemos como hemos manifestado muchísimas veces que los jóvenes deben de seguir formándose bien sea en formación profesional

hacía la universidad no podemos pensar que un joven que tiene dieciséis años porque haya terminado la enseñanza secundaria obligatoria lo podemos soltar de las manos

por un paternalismo mal entendido sino porque al país

que esos jóvenes sigan formándose y sobre todo en el territorio de álava nos conviene que esos jóvenes que habitan

en esas zonas rurales en las zonas no capitalinas yo creo que esto tiene que ser una política de país y comprendemos que la consejería de educación diga no pero yo no puedo echar sobre mis hombros toda esta carga

a la enseñanza obligatoria de acuerdo en el tema de transporte de acuerdo por eso creemos que tiene que intervenir la diputación pero si yo fuera la consejera no solamente intentaría llegar a un acuerdo con la diputación sino con otras consejerías del gobierno

algo tendrán que decir las consejerías que se ocupan de cosas como territorio

desarrollo social si para todos es importante que esos jóvenes se sigan formando como política de país y que la parte rural de álava no se siga despoblando tendremos que hacer un esfuerzo conjunto y en ese sentido va nuestra enmienda también quiero agradecer a todos los grupos que hemos hecho un esfuerzo por llegar

no ha sido posible pero no ha sido posible no porque no hayamos hecho todos un esfuerzo no porque el documento del gobierno no sea muy parecido al que vamos a aprobar el resto de los grupos son muy parecidos lo único que los diferencia y lo entiendo

es el grado de exigencia pero es que nuestra labor es ser exigentes

los dos documentos dicen casi lo mismo entonces agradeciendo

mostrado todos los grupos esperamos que este sea el documento

y sobre todo que no deje de la mano a los jóvenes que tienen que seguir formándose y que han superado ya la enseñanza obligatoria

tienen que sumarse la diputación si estamos hablando de álava la diputación de álava en otros sentidos las diputaciones pero también como política de país
como política de país otras consejerías muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea

legebiltzarkideok una vez más debatimos en este pleno sobre transporte escolar en esta ocasión sobre el servicio de transporte escolar que afecta a los niños y las niñas de dos años de los centros públicos

no es más que un síntoma de que es un tema que preocupa y que es necesario y urgente que abordemos sin embargo la moción que presentamos hoy desde elkarrekin podemos si bien es consecuencia de la interpelación realizada a la consejera de educación

sobre el transporte escolar pretende dar un paso más en esta etapa educativa hau da mozio honekin

esta moción pretendía aprovechar la ocasión y ampliar el debate a la calidad en la educación en el conjunto de la educación infantil es por ello

una moción para instar al parlamento vasco a no solo comprometerse a modificar la normativa del transporte escolar sino también a dar un paso más e instar a este parlamento a adoptar alguna otra medida que contribuya

del alumnado del primer ciclo de educación infantil de los centros públicos es decir medidas concretas que contribuyan a asegurar el derecho a una educación pública y de calidad del alumnado de cero

el primer ciclo de educación infantil es una etapa educativa básica y fundamental en el desarrollo humano hablamos de etapa educativa no de servicio público meramente asistencial entre los cero y los tres años se sientan las bases del aprendizaje que permiten desarrollar todas nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas disciplinas académicas como la psicología evolutiva y la pedagogía han obtenido numerosas evidencias científicas que respaldan la importancia de la escolarización desde edades tempranas la educación

en aspectos claves como la socialización y el desarrollo afectivo pero además contribuye a la detección e intervención precoz de trastornos del desarrollo

otras cuestiones que pueden además experimentar los niños y niñas a esas edades

educativa que además de servir para compensar y equilibrar desigualdades debidas al origen familiar social cultural sexual y de género entre otras es también un recurso fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar y por tanto para el avance de la igualdad en este sentido

nace con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar además la realidad

los factores que lo están provocando desde las ineficaces políticas de empleo hasta las escasas políticas de vivienda que no permiten a los jóvenes

pero también incluye la incertidumbre que provoca a las familias

o no poder asumir el pago de las cuotas de las haurreskolak

con estas cuestiones a qué nos estamos refiriendo qué barreras existen para las familias primero por un lado las cuotas públicas

no son asumibles para muchas familias hay familias que llegan a invertir la mitad de su sueldo

por lo tanto hay que bajar las cuotas y tal y como recogemos en nuestra iniciativa cumplir la resolución aprobada en el pleno monográfico

relativa al acceso al consorcio de las haurreskolak como un primer paso hacia la gratuidad y para profundizar en la progresividad para que sea finalmente gratis para las familias con ingresos inferiores a los dieciocho mil euros por otro lado

principalmente en los centros urbanos es una realidad por lo tanto realicemos un seguimiento de la evolución de la natalidad en euskadi municipio

las necesidades reales de las plazas escolares en la etapa de educación infantil y donde sea necesario que se amplíe la oferta

más aún mientras los centros privados subvencionados ofertan aulas matinales

en muchos centros públicos son las propias familias las que tienen que asumir este servicio que ayuda a la conciliación no lo décimos nosotras lo recoge

que destaca cómo muchas familias se ven obligadas que no eligen se ven obligadas a pagar una cuota extra para contratar a auxiliares de apoyo para la atención de los niños de cero dos años por lo tanto asumamos el compromiso

debe disponer del personal educativo necesario en lo que respecta a las aulas matinales y para ello para asumir este compromiso

una partida presupuestaria específica para la contratación de auxiliares técnicos educativos

hablábamos en nuestra moción lo que nos ha traído aquí el transporte escolar adaptemos el decreto

del alumnados de los centros docentes públicos no universitario de la comunidad autónoma del país vasco

del primer ciclo de infantil para garantizar la seguridad del transporte del alumnado de dos años sin que eso suponga ningún perjuicio para las familias usuarias de dicho servicio porque es curioso y ya lo dijimos en nuestra anterior intervención hace unos días en el pleno de control

de centros públicos cuando estamos hablando de escuelas públicas en los centros privados subvencionados con dinero público si no hay plazas se amplían los conciertos

ya se pueden quedar el curso siguiente ofertan servicios de aulas matinales y encima

no les afecta usted misma señora consejera nos ha facilitado los datos y el aumento de los ratios en los centros privados subvencionados no se debe a los repetidores la incorporación del alumnado tardío el agrupamiento familiar o los traslados recomendados por la inspección por casos excepcionales

el aumento de ratio se debe al apoyo constante de este gobierno a la educación privada y utiliza los centros concertados a modo de subcontrata

tendremos que seguir escuchando señora bengoechea que hay que asegurar la libertad de elección de centro de las familias décimos que lo que este gobierno tiene que asegurar es que todo el alumnado independientemente de su situación y de su origen disponga de una educación de calidad porque estamos hablando de derecho derechos a la educación de privilegios por todo ello hemos presentado esta moción una iniciativa que además de la modificación de la normativa del transporte escolar recoge medidas

en los centros públicos medidas que sin duda alguna contribuyen a desarrollar un sistema educativo vasco realmente equitativo inclusivo y de calidad

y la cohesión social medidas que no son invenciones de elkarrekin podemos sino que son propuestas recogidas en los informes del instituto vasco de evaluación

en base a evidencias y estudios previos realizados que así lo fundamentan mila esker eskerrik asko

porque no es precisamente la primera vez sobre el transporte escolar de los alumnos en este caso de forma muy específica sobre el transporte para los niños y niñas de dos años después había otras iniciativas que como acaba de decir edurne

pero nosotros nos ha parecido muy importante en este caso centrarnos específicamente en este asunto porque nosotros consideramos que el transporte escolar para los alumnos

independientemente de la edad de estos e independientemente de la red educativa a la que pertenezcan por ello nos parece que existen motivos para actuar

como son los niños y niñas de dos años se deben a los cambios estructurales de la sociedad y sobre todo de las familias vascas familias que tienen nuevas estructuras

el transporte escolar se convierte en un servicio necesario e imprescindible para dar respuesta a las necesidades de muchas familias familias que conjugan la incompatibilidad laboral y horaria con los horarios de los centros escolares además estos espacios de tiempo en el que los alumnos

no son meramente serviciales sino que también se deben considerar como espacios educativos como así se deben considerar también el horario por ejemplo de los comedores escolares por ello tantos los centros educativos como la administración educativa

y tienen la obligación de intentar dar una solución a las necesidades de las familias porque esto ayuda a la integración de los alumnos a la educación desde pequeños en igualdad de condiciones para todos sin exclusión de nadie en el acceso a la escuela dada esta situación y con la problemática que tenemos encima de la mesa parece evidente que hay que revisar y adaptar el decreto sesenta y nueve barra dos mil quince y buscar fórmulas para garantizar la igualdad de todos los alumnos ante este servicio de transporte escolar y desde luego que no se den diferencias entre las dos redes educativas es evidente que la normativa actual en materia del uso del transporte escolar

ante este servicio no garantiza lo suficiente el transporte a todos

de dos años es por ello que entendemos desde el grupo socialista que se deben hacer las modificaciones oportunas

y sobre todo de las familias porque las decisiones que se toman afectan a muchas de ellas tenemos que tener en cuenta que alrededor de un noventa y dos por ciento de los niños

por la conciliación familiar y seguramente muchos de ellos necesitan evidentemente el transporte escolar y tanto el departamento de educación como los centros escolares tienen obligatoriamente que buscar una vía porque también los centros están concernidos a la solución de este problema está muy bien dirigirse al departamento como responsable máximo

tienen que ayudar a buscar una vía una solución que no esté pendiente solamente de las épocas de los días o de los sitios vacantes en el transporte sino que los familiares y alumnos sepan que tienen garantizados este servicio por lo tanto una solución que se ajuste a las necesidades demandas realmente el transporte escolar constituye un factor que condiciona el derecho a una educación de calidad el derecho a la igualdad de oportunidades y condiciona también una educación que debe regirse por los principios de equidad y calidad educativa y eso no puede regirse porque unos alumnos puedan disfrutar de un servicio

no puedan hacerlo y garantizar esto entendemos que debe ser una prioridad y una obligación de la administración educativa por ello se insta en la enmienda que hemos

se haga primero un diagnóstico sobre la situación actual del transporte escolar y de las diversas casuísticas también se insta al departamento de educación a que mientras se adapta la normativa vigente analice en el seno de las comisiones de seguimiento de transporte escolar

y niñas de dos años y como he mencionado también al principio de mi intervención las nuevas situaciones familiares que se van produciendo requieren mejoras y modificaciones también en la regulación del servicio de transportes se barajan diferentes opciones en el departamento de educación

al alumnado de dos años en dicho servicio de transporte y debido a la conciliación familiar y a las nuevas situaciones debiera incluirse también en el decreto a los niños del primer ciclo

la inclusión de los alumnos de dieciséis dieciocho años como decía la señora bengoechea de zonas rurales por sus especiales circunstancias creo que hemos estado a punto

no difiere ni mucho menos tanto lo que se proponía por parte del grupo socialista y del grupo nacionalista y del resto de grupos no había una gran diferencia puedes poner el matiz

ni en las medidas que habría que tomar en eso existe una amplia coincidencia por lo tanto quiero lamentar

de ambas propuestas que hoy se van a votar no haya sido posible

conseguir ese acuerdo me quedo con lo positivo que es que hemos coincidido en el análisis de la situación hemos coincidido también en las medidas que hay que adoptar y hemos coincidido en qué colectivos debían estar incluidos dentro

vamos a quedarnos con lo positivo con que hay una amplia coincidencia hoy no ha sido posible ese acuerdo desgraciadamente pero es evidente que hemos recorrido un camino importante se ha conseguido un diagnóstico prácticamente unánime sobre la problemática que afecta al transporte escolar

de la calidad educativa de este país muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

para nuestro grupo el transporte escolar es un servicio fundamental que vertebra el amplio mapa de recursos que el departamento de educación pone a disposición de familias y de alumnado para atender adecuadamente a sus necesidades un servicio además que persigue el claro objetivo de hacer conciliar la vida familiar y la vida laboral

alumnos son transportados en las de quinientos cuarenta rutas por todo euskadi

en concreto del departamento de educación es el de garantizar la igualdad de acceso a la educación

superando además los obstáculos socioeconómicos que puedan tener y para ello pone a su disposición un sistema de ayudas y compensaciones en el cual se encuadra este sistema de transporte escolar a nivel normativo es el decreto

nos viene a debate cabe recordar que este marco normativo surgió por la necesidad de aunar en un mismo texto los diferentes elementos para prestar este servicio de forma adecuada y además hacerlo

y de equidad y dotando además de mayor seguridad jurídica tanto al alumnado como a las familias como a los propios centros educativos dekretu honek hainbat

está la de crear o proponer medidas que se estimen adecuadas para mejorar el propio sistema de transporte y otra sería la de las autorizaciones excepcionales que se recogen en el propio decreto concretamente en el artículo seis punto dos y en el apartado e honek

esto está directamente relacionado con el hecho de que ustedes ya han comentado también

del decreto no estén recogidos ya que en él siempre se habla del segundo ciclo

hasta este debate un marco regulatorio por cierto que no solo habla del ámbito

se extiende a la educación primaria y a la educación secundaria en cualquiera de los casos en este tiempo que ha estado en vigor el decreto en estos más de tres años

oportunidades de mejora a través de nuevas demandas todas ellas además que se han seguido a través de la comisión de seguimiento del transporte que se reúne periódicamente para analizar estas solicitudes

cuando respondía a las dos interpelaciones y a la pregunta

de este decreto en aras a mejorar la prestación del propio servicio y a complementar y clarificar los supuestos de aplicación

también simplificarlo administrativamente de forma que la interpretación que se pueda tener del mismo se reduzca y sea lo más sencilla posible al mismo tiempo también admitió que

autorizar en base a su independencia y a su autonomía de centro

en lo referente al transporte escolar de niños y niñas alumnado

creo que más o menos todos los grupos quizás con otros términos estamos comentando lo mismo

de bachillerato y formación profesional en entornos rurales en este caso

en la transaccional por recoger también este punto que en un principio no estaba previsto

como proponíamos hacerlo también con los alumnos y alumnas de dos años ustedes lo tacharon de

no recuerdo cuál era el adjetivo a nosotros no entendemos muy bien porque para un caso vale y para el otro no y finalmente también ustedes incluían la garantía de máxima seguridad en el transporte escolar

a un médico o en el departamento de salud se exige que

limpios no sé que el hecho de que se transporte a los alumnos de forma segura creemos que es algo

que además está regulada está regulada y los preceptos que en estos dos reales decretos

se prevé en estos dos decretos permanentemente está tratando de mejorar las sujeciones las condiciones los sistemas y monitorizando digamos cuáles son las últimas tendencias las últimas innovaciones para poderlas aplicar

el departamento de educación según su punto de vista lo mal que este gobierno lo hace lo mal que lo hacemos también

nosotros lo que hemos visto es a un departamento que ante una situación que se había generado ha sabido analizar las diferentes opciones que había para poderlo atajar y en este sentido creemos que ha actuado de forma correcta y no era ese es la pregunta que me hago no era ese el objetivo de hoy en definitiva

suscrita con el grupo socialista instamos al departamento de educación a dos cosas

sobre la situación actual del transporte escolar y también de las diferentes casuísticas que se pueden dar

esta modificación en el seno de la comisión de seguimiento del transporte que comentaba

de niños y niñas de dos años besterik gabe eskerrik asko

creo que nuestro grupo no está aquí para decir lo malos que son ustedes

ni nada creo que no se nos puede pedir una actitud más positiva y le voy a decir una cosa en educación que es el tema que con toda humildad yo llevo desde el primer día de mi intervención en esta tribuna

su responsabilidad llegaba en el momento de la tormenta perfecta con una crisis económica de la que empezábamos a salir con unas infraestructuras envejecidas y con un profesorado

que se iba a jubilar en un plazo muy pequeño pero eso creo que fue el primer día que subí aquí ustedes lo hacen

mejorables todo el mundo es mejorable y ustedes aunque no se lo crea también

a la población vasca pero no son mejorables vamos a ver es más en estos momentos yo le diría a la señora consejera intentando ponerme en su lugar que el problema

de la educación aparte de estar en la tormenta perfecta también es un problema de crecederas

digo esto en el sentido de que cada vez sofisticamos más la actuación cada vez nuestra actuación es más sofisticada y eso qué hace eso acarrea problemas suplementarios es que nadie tiene el noventa y dos por ciento de los niños

de dos años en toda españa solo nosotros fantástico pero eso crea unos problemas que te mueres es decir estamos con problemas de crecederas y que sí debemos exigir que se arreglen pero no desde el punto de vista

yo creo que todos tenemos que estar orgullosos de haber conseguido ese nivel del noventa y dos por ciento miren rápidamente les voy a contar una anécdota del señor azkuna del

un centro de salud a irun un centro de salud primaria el hombre me contaba desesperado me decía yo estoy abriendo

iba a desahogar los hospitales y es todo al contrario

más atascados están los hospitales por qué porque los centros de salud primaria detectaban muchísimas más

venía un poco desesperado entonces eso es lo que nos pasa cuanto más sofisticamos el sistema más necesidades creamos

ahora tenemos un problema con los dos años es que nadie sabe cómo sujetarlos en el transporte público ni la ley estatal ni la ley autonómica

es más en estos momentos es obsoleto hablar de edades se habla de tamaños y de pesos

hay que discurrir como nos hemos empeñado y hemos hecho muy bien en que el noventa por ciento estén escolarizados hay que discurrir cómo transportarlos

es que no hay ninguna normativa que nos diga cómo hacerlo y le he reconocido a la señora

pero es un verdadero problema un problema de lo que les digo de crecederas del sistema ya en el momento que me queda voy a dirigirme a la señora garcía no sabía que estamos aquí para debatir entre nosotros kontxo que hemos llegado a una transaccional pero solo le voy a decir un par de cosas yo no veo

o por qué ser incompatibles son absolutamente compatibles

que la presidenta del consejo escolar de euskadi nos habló de la necesidad de que la pública tiene que competir en calidad

para que esto sea así hay países de europa incluso zonas de españas en las que la pública compite en calidad

no lleva a los hijos a las concertadas mire es como en aquella época cuando íbamos al médico

ibas a un médico privado que estaba allí en un piso siniestro con unos muebles antiguos todos hemos pasado por eso yo

aunque sea está todo más limpio y eso es lo que tendría que hacer

competir en calidad y también hacer otra cosa que nos recomendó la presidenta del consejo escolar que ya le dije en la comisión usted no va a hacer muchos amigos que es

interna que es muy difícil que se cuestionen a sí mismos

bueno eso es todo y siento porque si alguien se vuelve a meter conmigo ya no tengo más oportunidades de contestar muchas gracias eskerrik asko

desde mi grupo parlamentario lamentamos que este debate se haya limitado a un ámbito de la educación infantil teníamos una buena oportunidad para ir más allá de la modificación de la normativa del transporte escolar y mejorar otros aspectos fundamentales

la calidad del alumnado de cero a dos años pero el resto de grupos parlamentarios han decidido no aprovechar esta ocasión para abordar cuestiones esenciales que sí hay que mejorar en lo que respecta a la educación infantil en euskadi como son realizar un seguimiento de la evolución de la natalidad en euskadi ampliar la oferta pública bajar las cuotas

entre las familias en escolarización temprana y asumir el compromiso público de incluir una partida en los presupuestos del dos mil diecinueve

técnicos educativos pero los portavoces del resto de fuerzas políticas parece ser que no están por la labor y nosotras

lo digo sinceramente entendiendo los tiempos plazos y formas

creemos que hemos venido a este parlamento y al resto de instituciones a ser valientes y a dar pasos más allá de lo establecido y por tanto con nuestra moción pretendemos dar un paso más

que como ya les hemos dicho nos parece una etapa educativa básica y fundamental en el desarrollo humano si bien hay que agradecer porque ya lo han

la predisposición de todos los grupos a la hora de negociar es una pena señor álvarez señora ubera señor pastor

que ustedes en bloque hayan decidido no ampliar este debate y abordar medidas concretas que son demandadas por diferentes agentes de la comunidad educativa y que sin duda alguna contribuyen a desarrollar un sistema educativo vasco

y de calidad y que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión

y que son además las que nosotras presentábamos en nuestra moción en lo que respecta al transporte escolar ya lo dijimos en esta cámara hace unos días

infantil como transportados autorizados y reclaman además

y que se revise bien la normativa de seguridad vial y las características técnicas de las homologaciones para elkarrekin podemos es el deber del departamento de educación y de este gobierno facilitar la conciliación a las familias y ofrecer calidad educativa y a pesar de lo que usted piensa señor álvarez este departamento

muy lento y nosotras actuamos con responsabilidad y coherencia porque el transporte es solo una parte y además queremos que quede constancia aquí de esto así que de las enmiendas y propuestas de transacción nos parece la más completa y concreta la que hemos firmado junto con el grupo popular y eh bildu que como ya

a las necesidades reales del alumnado en coordinación con los centros educativos públicos y que de esta manera ningún alumno o alumna en el país vasco se quede sin transporte escolar

rurales y sin olvidarnos por supuesto de garantizar el transportes a todas aquellas jóvenes del entorno rural tanto en bachillerato como en formación profesional a través

interdepartamental e interinstitucional mientras se realiza

un diagnóstico de la situación y se estudian las necesidades reales existentes en la actualidad

es fundamental poner en marcha medidas provisionales para responder a las necesidades urgentes del transporte escolar del alumnado del primer ciclo de educación infantil durante

mientras resolvemos lo que tenemos que resolver es fundamental que tomemos las medidas oportunas para darles una solución a las familias porque ellas mismas nos han comunicado

y por último tal y como demandan las familias y desde el sentido común revisar bien la normativa de seguridad vial y las características técnicas de las homologaciones

acudan a sus centros en condiciones de seguridad óptima señor álvarez no viajarán seguros cuando la seguridad fue la razón por la que se prohibieron a los niños y niñas de dos años subir al autobús

que fuera bajo la responsabilidad de los centros públicos por esto nosotras enmendamos en esta cuestión y nos parecía muy importante

los alumnos y alumnas fueran a los centros y a las escuelas de forma segura eskerrik asko

bueno rápidamente yo entiendo que desde la oposición se tenga que ser exigente es lo que tienen que hacer

si me encontrara el papel de oposición y es lo que hicimos cuando ejercimos de oposición pero también hay que tener en cuenta que la vida no son blancos y negros son grises y matices

y por eso se intentó hacer un acercamiento importante porque no es verdad que desde los grupos que estamos apoyando al gobierno nos negáramos a debatir sobre los temas

se incorporó el tema del primer ciclo de educación infantil como un objeto de estudio se incorporó también la problemática de los chavales de dieciséis y dieciocho años de zonas rurales se incorporó la posibilidad

a la revisión del modelo de transporte todo eso se puso encima de la mesa llegó un punto en que no se consideró suficiente y no se pudo llegar al acuerdo pero

se parece muchísimo los textos que se barajaron por parte de unos y otros y yo sigo pensando que podía haber sido posible el acuerdo bueno quizás en un momento dado se llegó a una situación de determinado vértigo si no parece que no ejerzo el papel que me corresponde como oposición y creo que se puede ser osado

pero también hay que saber además ser útil porque si no se queda solamente en una expresión

para que se pongan en una foto y luego hombre

pero hay veces en las que las cosas no se pueden plantear como si esto fuera un puchero

o nos indigestamos y a veces hay que plantear las cosas con comida limpia

y después la otra porque hay más días que ollas siguiendo el símil gastronómico y ese tema que usted plantea y que a nosotros también nos parece interesante habrá que debatirlo

no me queda ninguna duda de que lo hará pero yo creo que este era el momento que era y este debate surgió

una inquietud por parte de algunas familias respecto a que los colegios en este momento cuando ellos tenían que asumir la responsabilidad se negaban a tramitar el transporte y me alegro de que usted haya hablado de la seguridad porque a mí me estaba sorprendiendo que hasta la fecha nadie hablaba de ese tema y yo ahora no tengo hijos en edad escolar pero a mí me hubiera preocupado mucho

y hoy por hoy que yo conozca no existe un sistema actualmente homologado que pueda cubrir esa necesidad de ese cumplimiento legal de medidas de seguridad tendrá que aparecer en algún momento no existe todos hemos hecho un poco mirar para otro lado y esperando que no pase nada pero es evidente que los chavales los pequeñines

tampoco están cumpliendo todos los requisitos de seguridad que sería deseable que cumpliesen

habrá que adaptarlo ahora mismo no hay ningún sistema homologado al que se le pueda dirigir para decir acondicione usted todos los autobuses de transporte escolar que están en la red que son muchísimos

yo creo que por responsabilidad sería lo primero de lo que nos tendríamos que ocupar eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak álvarez jauna zurea da hitza

fíjese si somos mejorables que de hecho el departamento de educación de la mano

presentó un plan de mejora del sistema educativo con diferentes retos diferentes objetivos concretos y además con plazos concretos e indicadores fíjese si somos mejorables y si tenemos además ese afán por mejorar cada día

hablaba usted de que ese noventa y tres por ciento de escolarización en estas franjas de edad puede suponer un peligro para nosotros desde luego es un orgullo más si cabe

cincuenta y ocho por ciento de media en esta misma franja de edad a nivel estatal también nos choca un poco que a usted

y mientras tanto su socio hoy en este tripartito que han creado

para esta iniciativa exija en uno de sus puntos en la moción original que

la escolarización desde luego nos llama la atención que usted y elkarrekin podemos contrasten tanto

hayan llegado a un acuerdo que han firmado a la señora garcía pues

y al hilo de esto último que le comentaba a la señora bengoechea en torno a estas campañas de escolarización temprana entre colectivos vulnerables y también al hilo de que

que usted además como presidenta de la comisión de educación lo sabe de primera mano que

se ve que parece que toda la responsabilidad todas las responsabilidades son del departamento nosotros creemos que es algo compartido más si cabe

pero es un departamento que queda bien cerca y me consta y entiendo que no somos el único municipio que lo hace

les ofrecemos todo tipo de información relativa a los centros educativos oferta educativa incluso en muchas ocasiones ponemos en contacto a centros con familias

y esto viene al hilo de que no todo debe de caer del tejado del departamento de educación es una responsabilidad compartida que aunque y más en la medida en que somos

pertenecemos a administraciones públicas la responsabilidad es compartida y por parte de todos y de todas

sobre el cumplimiento de la resolución del monográfico de infancia y familia de este mismo pleno yo me siento

me consta y de hecho dudo mucho que nadie de este gobierno se tome a la ligera las resoluciones de este parlamento mucho menos cuando estamos hablando de infancia y familia y del reto demográfico

y demás consejeros y consejeras de este gobierno han dicho que es un reto de país dudo mucho que nadie

trabajando y estudiando las vías para poder cumplir con estas resoluciones en definitiva

buenos días gracias señora presidenta señores consejeros señorías el pasado cinco de octubre interpelábamos a la señora consejera sobre

y las consecuencias que está teniendo en nuestra comunidad autónoma señorías decir en primer lugar cómo se desata está situación anunciaba la señora ministra

en españa argumentando que es para evitar impacto ambiental y sobre todo por las partículas contaminantes que respiramos en las ciudades derivadas de estos motores y apelando como no a los efectos que esto puede provocar en la salud de los ciudadanos está claro y tenemos datos concretos estas palabras de la señora ministra

ya tienen datos concretos se ha estigmatizado a los vehículos de gasoil y se ha sentenciado a todo un sector esta guerra desatada contra el diesel ha provocado un incremento de las emisiones medias de dióxido de carbono de los vehículos nuevos y esto porque casi toda la cuota de venta

que han perdido los motores de gasóleo lo han ganado los de gasolina que generan más ce o dos y ya lo advertíamos en la interpelación

que sus rivales de gasolina pero ya están estigmatizados

sin ningún dato de estigmatizarlos y como en euskadi el rechazo al gasóleo es todavía más radical nos hemos situado como digo en el país vasco en la peor situación de toda españa en esta evolución

entre enero a septiembre de este año se han disparado a ciento veintiuno gramos por kilómetro recorrido el país vasco

los que más ce o dos emitimos el comprador cambia el diesel por la gasolina el híbrido es el único como tecnología alternativa que se está matriculando

y decía la señora consejera la criminalización del diesel daña a euskadi esto después de casi tres meses pero sabiendo esto no ha hecho el gobierno nada nada y además callar hasta la semana pasada salvo el diputado general de álava que tímidamente pedía certidumbre para que la industria automovilística y el sector de automoción no se vea dañado y decía que un elemento fundamental para la economía es para la estabilidad fiscal

certidumbre a las empresas y esto está faltando al gobierno de españa transmitir seguridad y certidumbre porque efectivamente

emitimos por kilometro recorrido también afecta de lleno a la industria automovilística y el sector de automoción del país vasco y especialmente en vitoria a la factoría mercedes

de lo que está pasando en el país vasco la cuota en las ventas de motores de gasóleo se ha desplomado

cinco puntos por debajo de la media nacional que se sitúa en el treinta y siete por ciento esto nos afecta de lleno afecta de lleno a la factoría de mercedes el ochenta y cinco por ciento de los vehículos que salen de las líneas de montaje son diesel de última generación en este momento la dirección alertaba del riesgo de que esta crisis deje de ser algo coyuntural para pasar a convertirse en estructural factoría de mercedes que ya parado cinco días en octubre también ha acordado parar en noviembre otros cinco

en el aire porque señorías

eso que tanto repiten quién tiene capacidad para comprar un vehículo eléctrico son ustedes todos millónarios tal vez cuánto cuesta un vehículo eléctrico cuánto cuesta su mantenimiento cuánto contaminan las baterías tenemos técnicamente medios para poder hacer esa transición que ustedes les oigo que piden

que tenemos con qué producimos electricidad señorías ayer el mix energético en el país vasco era nuclear veintidós coma seis por ciento veinte coma veintiséis por ciento eólica dos coma setenta y siete por ciento

el seguimiento de la energía de la demanda con esto qué generamos electricidad

qué es estamos contaminando claro y esta es la solución que tienen ustedes nosotros presentamos una moción a esta situación y la presentamos porque entendemos que tenemos cinco mil seiscientos trabajadores afectados por la guerra del diesel en mercedes porque tenemos cuarenta y cinco mil en el sector de automoción en álava datos son tremendos para la población de doscientos cuarenta mil habitantes que es vitoria y su entorno

en riesgo seiscientos ya han ido al paro en este mes y este impuesto mejora las emisiones no

nos empeoran las emisiones y nos llevan a encabezar la lista de mayor emisión de ce o dos por kilómetro recorrido lo dicen todos los expertos la solución

más viejos está claro los vehículos diesel de nueva generación con pocas emisiones son imprescindibles en el periodo de transición pero ya los

que el diesel en general tiene los días contados esta es la irresponsabilidad de un gobierno

el coche eléctrico el coche eléctrico parece que va a ser el futuro pero

estamos en pañales no tenemos infraestructura son carísimos tienen poca autonomía les decía y les digo que presentamos una moción que quiere y que

para que renuncie de forma inmediata a poner en marcha un impuesto al diesel por el grave daño que puede causar a la industria automovilística del país vasco especialmente en álava y en el conjunto de españa porque el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que

que genera una enorme incertidumbre y pone en riesgo inversiones puestos de trabajo

socioeconómico en el país vasco y especialmente en álava el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que junto con los sectores afectados apueste por una transición ecológica

y que contemple la puesta en marcha con carácter urgente de un plan

ocho diez podemos hacer un plan renove para los vehículos diesel vamos a recaudar más tenemos el dinero para poder hacerlo solo falta la voluntad las ganas de hacerlo y también tenemos el cuarto punto en el que el parlamento vasco considera oportuno garantizar la estabilidad fiscal

que son fundamentales para apuntalar mantener y favorecer el desarrollo económico de nuestro territorio e instamos al gobierno vasco

la realidad desde el conocimiento con datos precisos para que entre todos contribuyamos a una movilidad cada vez más sostenible desde el punto de vista medioambiental

la verdad a los ciudadanos a esta moción se han presentado enmiendas alguien me ha dicho que hay una enmienda de transacción no la he visto

agradezco el detalle porque no la he podido observar tal vez contradiga a sus enmiendas no lo sé por ejemplo grupos

hacen un primer punto en su enmienda que dice el parlamento vasco muestra su preocupación por la incidencia que el debate

ah hace incidencia no sabíamos es la primera noticia salvo el diputado general y la señora consejera la semana

menos mal que lo reconocen pero reconocen máss porque insta a los distintos agentes públicos

irresponsable al gobierno de españa irresponsables ustedes que lo han nombrado porque ese gobierno irresponsable que ustedes dicen aquí lo han nombrado ustedes además

porque para no estigmatizar injustificadamente sectores industriales

pues muchas gracias porque coinciden plenamente con nuestra iniciativa creo que aquí

en términos reales es decir el impuesto es negativo es nocivo y además la irresponsabilidad del gobierno de españa ha estigmatizado al

por lo tanto tanto los de nueva generación como los de antigua están estigmatizados todos nos han hecho un pan

a adoptar medidas que den seguridad al sector de la automoción oiga que tienen un gobierno

no es su gobierno a qué administraciones competentes apelan es una iniciativa en abstracto o sea que tienen un gobierno a qué están aquí no no están para gobernar para qué están

para qué están si no saben dar soluciones y ustedes tampoco les dicen que pueden dar soluciones

pongan en marcha alguien un plan renove que permita la mejora del parque automovilístico reconocen que hay que hacer un plan renove pero a ver quién lo pone en marcha

de verdad es que ejerzan ese autogobierno que tanto promulgan

ejerzan que tienen tienen medios y medidas tienen posibilidad de hacerlo y tiene el recurso económico que es lo que falta detrás de un plan renove

nos dicen que las administraciones públicas estatales europeas

señorías el grupo nacionalistas vascos yo creo que deben pensar en los vascos

no están pensando en los vascos están pensando en sus ansias por conseguir esas transferencias que les han prometido en eso están no están en otra cosa

porqué su carga de trabajo la carga de trabajo de la empresa mercedes ha bajado porqué ha bajado porque hay un gobierno irresponsable que ha anunciado que el diesel va a desaparecer por eso

y es que no es el impuesto es un gobierno irresponsable que sin mirar las consecuencias habla tiene incontinencia verbal y hace daño

ustedes son corresponsables de lo que está pasando

que va a repercutir en todo el sector servicios y eso nos encarece y nos empobrece

con sus acuerdos que firman bildu también ha hecho una enmienda y reconoce también

y para las cincuenta familias directamente dice que tiene efectos regresivos

negativos que nos empobrecen y nos han tocado el empleo

eso es eso no sé si es regresivo o es un palabro para desviar siguen con la transición energética que estamos de acuerdo pero oiga señorías dónde está quién puede comprarse un coche eléctrico ustedes pueden comprarse un coche eléctrico pero otros no la mayoría de los currelas

para su trabajo no pueden comprarse un coche eléctrico porque qué autonomía tiene el coche eléctrico pero lo mejor la enmienda de bildu es el punto sexto que dice el parlamento vasco urge al gobierno

con el fin de evitar que las empresas del sector utilicen este debate para empeorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras oiga mire ustedes están en madrid pueden votar que no al impuesto y no se aprueba entonces ahora no venga a estigmatizar a la empresa

un impuesto que le va a mermar la carga de trabajo porque ustedes lo van a votar a favor ustedes han votado al gobierno y ustedes van a votar a favor del impuesto y dice que tal vez la empresa aprovecha este debate cómo que este debate no es que

ya le ha mermado la carga de trabajo ya hay trabajadores que ven en riesgo su puesto de trabajo

que no solo es mercedes que es todo el sector de la automoción

en vitoria y ustedes ya ponen la duda en la empresa

qué se llevan a cambio cuéntenlo porque claro

suponiendo que hombre mire yo creo que es una pasada poner la duda en la empresa y luego ya

para la gestión de españa pues ustedes están disfrutando están encantados con los socialistas y además estos señores les aplauden pues oiga

no hay nada aprovechable de su enmienda ya lo siento muchas gracias eskerrik asko

es falso es falsa esta relación que establece el partido popular entre una posible subida de los impuestos al diesel con la situación

es una relación falsa y además es falso que una posible subida vaya a tener un efecto socioeconómico grave

es curioso que esta moción haga referencia a los efectos sobre la economía y no sobre las personas porque si algún efecto puede tener este debate tanto del diesel

no se dice nada sobre las personas por ejemplo que sufren la contaminación ocasionada por el diesel

sobre los cientos de miles de personas que han comprado vehículos diesel que tienen más emisiones

y no se dice absolutamente nada sobre los trabajadores y trabajadoras eventuales de las fábricas automovilísticas que como consecuencia de esta serpiente de verano

la palabra mercedes pero sin embargo en todo su discurso sí trasciende porque usted sabe la importancia que tiene mercedes en araba es especialmente grave jugar de esta manera con los conceptos mercedes el año pasado tuvo una producción de vehículos récord en su historia cien mil ciento cincuenta mil vehículos por primera vez en su historia el año que viene va a superar este record y va a batir

mercedes esta mejor que nunca y la reducción que se ha hecho en los pedidos es escasamente de un dos por ciento escasamente de un dos por ciento

pero es que además mercedes exporta el noventa por ciento de su producción es decir que un impuesto en españa no le supone un impacto reseñable en absoluto en absoluto pero además mercedes uno de cada tres vehículos que produce es de lujo

tres veces más que cualquier vehículo eléctrico quien compra un vehículo de lujo aunque sea de diesel por supuesto que tiene capacidad adquisitiva para pagar los impuestos aunque se le suban pero no es esa la cuestión

la cuestión es porqué mercedes porqué mercedes ha reducido sus perspectivas de producción justo en septiembre y justo después de que la ministra hiciera las declaraciones respecto al impuesto al diesel por qué

que la ministra hizo esas declaraciones anfac sacó un comunicado alertando de graves consecuencias

por qué justo el mismo día de la ministra anfac que es el lobby de la automoción

y justo después se empiezan a producir en la mayoría de las plantas automovilísticas de españa anuncios de recortes de empleo es el único objetivo de esos recortes es condicionar este debate y es algo que

legítimo pero no es real no existe este debate real el señor otero en su enmienda

una referencia expresa a las condiciones laborales de mercedes y ya que estamos analizando a mercedes

mire esta reducción de apenas el dos por ciento en la producción de mercedes efectivamente va a suponer que en torno a quinientos habituales se vayan a la calle mercedes tiene una política permitida por todos los gobiernos la diputación incluido el gobierno vasco mediante la cual mediante la cual los eventuales cobran

diferente sueldo la excusa es que tienen

mediante la cual durante siete años durante siete años tienen que ir digamos ganándose el mérito

qué hace mercedes de vez en cuando cuando ya se están acercando a esos siete años los despide y contrata a otros

que han denunciado los sindicatos durante varios años ya a la inspección de trabajo del gobierno vasco también lo que va a hacer mercedes

supuesta reducción de la plantilla es despedir a doscientos personas y sustituirlas por otras eso exclusivamente es mejorar sus beneficios que ya son pingües y que tampoco hablamos de ellos y no procede hoy hablar de ellos y sustituir a doscientos eventuales

eso es la consecuencia que va a tener y en su moción no dice nada sobre estas personas

usted no sabe que mercedes tiene una bolsa de trabajo por la cual si no hay trabajo un año al año siguiente digamos recuperan esas horas no se van a la calle los fijos en absoluto en absoluto pero bueno

centrarme en qué dijo la ministra de transición ecológica cuando dijo que

los días contados dijo tres cosas dijo que además de que tenía

dijo también que el proceso se tiene que acompañar con facilidades que permitan ir cambiando el patrón de nuestros vehículos privados hay que mejorar el parque automovilístico ya lo dijo la ministra

la unión europea lleva diez años diciéndonos que la imposición del diesel que tiene españa está muy por debajo de la media

y que no es sostenible tenerlo así ahora podemos discutir cómo se tiene que hacer esa subida de impuestos porque evidentemente quienes han comprado un vehículo diesel no tienen por qué ser quienes paguen eso y sobre todo las rentas más bajas de ahí la palabra regresivo del señor otero

no puede ser que un impuesto diesel un nuevo impuesto al diesel realmente suponga una mayor carga para quien menos tiene porque si los vehículos diesel son los más baratos en efecto

ahora mismo sean quienes paguen en exclusiva el pato de esta situación pero la situación real es que el diesel contamina más y lo voy a matizar

que los motores tradicionales tiene un mayor potencial contaminante y además tiene una carga adicional y es que los fabricantes de motores diesel han hecho trampas

quienes han establecido el estigma son los fabricantes de motores diesel que

porque el otro día el señor imaz en un artículo sorprendente cuanto menos decía

han reconocido hacer trampas volkswagen renault magda honda nissan mitsubishi y mercedes

también mercedes por lo tanto el estigma lo establecieron los fabricantes

que contaminan más de lo que decían contaminar y quienes ahora están atrapados por eso son quienes compraron esos vehículos pero voy a ir terminando mi primera intervención diciendo que

sobre el efecto del impuesto en la industria automovilística es falso hay otro debate

y que son uno el encarecimiento de los combustibles y dos la escasez de materias primas en efecto no vamos a poder sustituir todos los vehículos de combustión por vehículos eléctricos y eso lo están asumiendo ya casi todas las consultoras tecnológicas que dicen que el mercado de la automoción mundial se va a contraer como mínimo un veinte por ciento y para eso sí tiene que estar preparada nuestra economía ese sí es un debate real

no se está afrontando de ahí que nuestra propuesta que por cierto me alegro de que hayamos conseguir transaccionar porque la propia señora tapia lo asumió

pensar en planificar su transición su reconversión futura para poder mantener el empleo y la capacidad productiva y dedicarlo

este es un debate estéril la cuestión es si lo conseguimos convertir en un debate útil y productivo desde luego hablar de la relación entre el diesel

es un debate falso utilicémoslo al menos
para planificar que el futuro que ese sí es un debate que necesitamos gracias eskerrik asko becerra jauna

gracias presidenta y buenos días a todos y a todas

creo que merece un análisis serio y de contenido sin utilizar a ninguna empresa concreta y sobre todo sin contar la verdad de lo que sucede en ella

sin sostén de criterio económico técnico y medioambiental estamos ante una nueva apuesta política de un gobierno progresista que entiende la necesidad de afrontar un nuevo productivo en el que se dedicará una especial atención

de ahí el espacio del que surge esta propuesta en el gobierno de españa que es el ministerio de transición ecológica algo que nunca hubiera sucedido en un gobierno de derechas

es enfrentarnos a los problemas de equidad y de justicia social

decisiones económicas han cambiado las tome quien las tome un ciudadano una pyme una gran corporación una administración local o un gobierno autonómico

el tema del modelo energético entendiéndolo como un paraguas global los socialistas apostamos por un modelo renovable y bajo en carbono queremos que esto llegue de una forma rápida y a través de una transición energética lo más consensuada posible con todos los agentes implicados en la propuesta que hoy nos trae el partido popular se insta directamente al gobierno de españa y a su presidente ya en el mes de junio

también es cierto que se dejaba la puerta abierta a subir el impuesto del diesel de una forma escalonada esta medida está dentro de una apuesta clara por la política medioambiental para impulsarla se planteaba una nueva fiscalidad en la que se incluye la derogación del impuesto al sol

muy lejos esta política de la del partido popular todas estas medidas ninguna nueva

rajoy por lo tanto esto no es ninguna ocurrencia señora lópez de ocariz desde el año dos mil doce la oms considera al humo del diesel cancerígeno tan comprobarse de una forma científica también hay informes sobre esto huyendo de ese doble lenguaje

antes de hacer determinadas afirmaciones una de las razones para defender la necesidad de reducir

una cuestión de defensa del derecho a la salud no podemos mirar para otro lado hasta que sea demasiado tarde debemos afrontar la realidad con serenidad rigor y equidad social

en el marco de una modificación de fiscalidad verde este es un asunto que va más allá de la industria automovilística que por supuesto

e incluso va más allá de lo que tiene que decir el ministerio de hacienda competente en el tema de tributos

la fiscalidad es competencia del ministerio de hacienda que lidera todas las iniciativas sin perjuicio del apoyo que se ofrece desde el ministerio de transición ecológica la fiscalidad verde debe ser una señal clara para orientar a los agentes

y resiliente al clima en euskadi pronto la ley de cambio climático será una realidad que marque un itinerario y proponga algunas exigencias en españa

y se está trabajando desde luego de una forma coordinada con el ministerio de hacienda para que las herramientas fiscales sean aceleradoras del cambio de modelo económico como decía este mismo lunes en un desayuno la ministra rivera la descarbonización del transporte

y es conveniente que los fabricantes españoles se posicionen en la producción de vehículos de cero emisiones si no quieren perder la competitividad en el futuro respecto a los fabricantes asiáticos porque no se puede evolucionar sin mirar lo que se sucede en el mundo

también en la electrificación de la demanda tanto por el impulso dado al desarrollo de baterías como por el hecho de que el incremento de cuota de mercado de este tipo de vehículos supondrá un crecimiento

un trabajo urgente es dotar al país de la infraestructura de soporte y recarga necesaria e impulsar todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico

para varios sectores estratégicos como lo son el energético el de la automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico como energético y medioambiental desde luego no podemos vivir al margen de un proceso de cambio

este tipo de procesos entendemos que son progresivos y requieren coordinar un conjunto de medidas por un conjunto de administraciones desde lo local a lo internacional y esto no es poner el ventilador es que esto no solo lo decide el gobierno vasco o lo decide españa en esto

por supuesto este proceso ha de acompañarse con facilidades especialmente en colectivos especialmente afectados de ahí el término regresivo al que usted se refería desde el principio los socialistas hemos abogado porque la necesaria e ineludible transición ecológica sea también justa y equitativa y estamos

además en este contexto no podemos obviar que la comisión europea ha pedido expresamente cualquier propuesta o medida en estudio que permitan avanzar

de la política de calidad del aire y eviten que se incentive la adquisicion

no olvidemos también que la comisión europea critica a españa por la baja recaudación que logra la imposición ambiental y esto desde luego no se lo dice al gobierno de sánchez

bruselas reitera que la fiscalidad relativa a este concepto sigue estando por debajo de la unión europea españa tendría que elevar su recaudación para situarse a este nivel además infinidad de ciudades europeas están planteando ya o tienen en

mire señora lópez de ocariz a todos nos preocupa la situación de mercedes benz

que supone fundamentalmente para álava esta empresa pero hay que contar las cosas como son y se está manipulando usted dice que hablemos con los currelas a dicho de mercedes desde luego mi grupo parlamentario ha hablado con los trabajadores de mercedes ha hablado con los sindicatos y ha hablado con la empresa y usted no está contando la verdad está manipulando

que algunas de las medidas que adopta mercedes en vitoria no están relacionadas con el impuesto que anuncia el gobierno de españa usted sabe que mercedes debido a sus niveles de producción que le ha hablado el señor becerra se planteó ya el hecho de aumentar

que no ha parado ni un día su funcionamiento para llegar al objetivo final de la empresa usted sabe que una empresa que está

por el hecho de que baje un porcentaje mínimo no deja de tener beneficios usted sabe que esos contratos que se dice que se han perdido a partir del diesel no es verdad

especiales en mayo que tenían fecha de caducidad el treinta de septiembre

y no tiene nada que ver ese fin de contratos con el tema del diesel y ustedes están intentando relacionar todo con este anuncio del gobierno de españa

no han asumido que están fuera del gobierno creen que todo lo que sucede es usted ha dicho que es un gobierno irresponsable y no en lo que tiene que ver con energía

está tomando decisiones reclamadas desde hacía mucho tiempo por todo lo que tiene que ver con el medio ambiente con la ecología y con lo que viene mandatado por europa por cierto mandatado por europa y que el partido popular miraba para otro lado unos nos preocupamos de los trabajadores y de lo que tiene que ver

y otros pues bueno en fin trabajan en otro tipo de intereses pero no se manipule la gasolina tenía un impuesto y el diesel no

que la ecología el medio ambiente y el desarrollo de la empresa automovilística va en una dirección que aparte de que apunta a europa hay una apuesta por un cambio de proceso energético que ustedes no aceptan ya hemos visto cuáles eran las propuestas que llevaba el gobierno del señor rajoy y que ahora con un gobierno progresista y con apoyos de partidos de izquierdas

que hizo un partido de derechas pero no manipule porque el impuesto del diesel no es lo que usted nos ha contado nos ha hablado de un informe yo le puedo presentar muchos informes que hay de europa creo que debiéramos ser partidos vascos responsables y no utilizar la situación de una empresa concreta para contarnos otra realidad porque le diré que es verdad que en álava

pero en valencia tiene mucho más la renault en aragón tiene mucho más en cataluña porque

y mire lo que están opinando en el resto de comunidades autónomas y desde luego no utilice el nombre de una empresa para beneficio propio porque no sé qué me da
que los trabajadores no opinan lo que opina usted eskerrik asko rojo

debate como piedra arrojadiza y con ánimo de

y sacar ventaja de situaciones que pueda ser perjudiciales para algunos sectores pues efectivamente

de todos los agentes públicos y privados conseguiremos estigmatizar y hacer que el debate no se desarrolle de una forma responsable serena y con rigor que es lo que pedíamos y también en la enmienda transaccional que hemos firmado se recoge se refería usted también al mix energético de euskadi y tapia decía que no había hecho nada yo creo que la consejera tapia tanto en la interpelación que usted le formuló en la comisión de desarrollo económico el veinticuatro de septiembre cuando se presentó el plan de movilidad sostenible y si no

meridianamente claro y manifiesta su preocupación por esta cuestión una y mil veces y siempre dice que los pasos que se tengan que dar tienen que ser pensando siempre en las consecuencias que todas las medidas van a tener en el ámbito privado también recuerdo que en esa comisión

disponible pero sí tenemos los videos y repasando decía es necesario introducir aspectos fiscalidad y otras actuaciones en favor de los vehículos que sean menos contaminantes pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias y tener por tanto tomar por tanto las medidas de forma escalonada para que no afecte

a privados ni a públicos de forma que no puedan ser asumidas esas medidas

desde luego siempre se ha manifestado en este sentido usted estaba apelando propuesta en la moción se refiere a la necesaria estabilidad fiscal y usted nos oirá una y mil veces a nuestro grupo apelar a la necesaria estabilidad hombre pero tienen narices permítame la expresión

que desde su grupo están pidiendo y diciendo que la fiscalidad vasca tiene que modificarse en algunos sentidos cuando acabamos de llegar

hace poquísimo a un acuerdo esté apelando a la estabilidad fiscal en esta cuestión que pues fíjese usted cuando tiempo lleva como está

fuera a europa en el tema de la fiscalidad decía usted señora lópez de ocariz bueno yo creo que eso tampoco tiene se lo han comentado ya las peticiones de europa para que se avance en esta materia no son de ahora cuando rajoy estaba en el gobierno también la comisión

a españa por la baja fiscalidad sobre los impuestos medioambientales y en especial sobre el diesel los impuestos medioambientales

titulares en prensa como estos que estaba en la agenda de rajoy de que rajoy también aumentará el impuesto del diesel en la financiación autonómica

este debate y yo creo que es importante aclarar algunos conceptos no hay un nuevo impuesto becerra usted decía el nuevo impuesto sobre el diesel no hay un nuevo impuesto el impuesto

se establece en europa en la unión europea con una directiva y lo que pasa es que el estado hace ejercicio de su capacidad de poder incrementar el tipo mínimo porque es la única capacidad que el estado en su caso tiene

en el caso de los impuestos especiales es decir los tipos mínimos los establece la unión europea y puede subir digamos que lo que hasta ahora estaba era bonificado no es que ahora se establezca un nuevo impuesto sino que estaba bonificado y lo que se hace es

y que se rige por el principio de quien más contamina más paga esto quiere decir que este impuesto tendría que ser tendente a cero por qué

que se vayan adoptando medidas más medioambientalmente sostenibles no tendría por qué haber esto pero en la medida en la que esa tendencia a cero no llegue a su límite pues quien más contamina

del estado lo que está proponiendo es incrementar ese tipo actual que existe para equiparlo progresivamente en unos años a la gasolina

el diseño regresivo se refería usted señor becerra el diseño no regresivo de los impuestos especiales no es facultad

estos impuestos los define la unión europea y lo único que puede hacer es subir por eso nosotros en la propuesta que les hacíamos para llegar a una enmienda transaccional les decíamos que no se puede diseñar un impuesto regresivo eso se escapa de la facultad y de la competencia del estado

para que de alguna forma se pueda avanzar o compensar en su caso si hubieran efectos regresivos por este tributo y en cuanto al carácter finalista también que les estábamos insistiendo

decían que todo se pudiera destinar a este tipo de medidas medioambientales este no es un impuesto finalista lo que se hace es se recauda todo y se destina

distintas y desde hay una parte se destinará entre otras a las medidas que proponemos en nuestra iniciativa yo

se pudieran crear que se pudieran poner en marcha eta

se ha dicho aquí ya no es una cuestión de un nuevo impuesto

europeo y entiendo que también tenemos aquí de quien contamina paga

sabido y sabemos es que con el diesel estaba pasando algo anómalo vamos a decir es decir que aunque es muy cuestionable que ustedes algunos vayan a decir que tras la norma euro seis

lo que está claro es que las emisiones del parque diesel actual está provocando más contaminación que el de gasolina en cualquier caso no tiene mucho sentido que se pague

de impuesto especial directo por el diesel como estaba pasando y esto

es que ahora ustedes señor lópez de ocariz vienen a alzar la bandera del no

al impuesto al diesel o no a la equiparación o no a lo que yo qué sé qué pero mientras ustedes han estado en el gobierno han ido pidiendo una serie de informes

el famoso informe lagares sobre las posibilidades de reforma fiscal que se podía hacer que pidió montoro en dos mil catorce concluía muy claramente que

del litro de diesel hasta niveles cuanto menos equivalentes a los del litro de gasolina y debería elevar aún más el precio del diesel si las diferencias en los costes de contaminación local no están reflejadas en el precio de los combustibles

esto mismo porque lo sacaron de ahí no es ya que viniera después en los informes de la ocde

lo dijo el comité de expertos que convocaron ustedes para la transición energética

de todos los grupos menos el nuestro y que votaron a favor y también decían lo mismo que tiene que haber una equiparación porque como poco contaminan lo mismo porque contaminación no es solo ce o dos son óxidos de nitrógeno

etcétera a igualdad de contaminación tenía que estar pagando lo mismo pero aquí estaba pasando otra cosa y está pasando otra cosa que es

del diesel y es que un impuesto medioambiental que tiene que estar destinado efectivamente a la mejora de la calidad medioambiental de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas no estaba haciendo utilizado ni bajo la premisa de quien contamina paga ni con ese objetivo sino que estaba

y empujado evidentemente por el lobby automovilístico

en europa para compensar un problema de competitividad que tenía el diesel con respecto a la gasolina supongo que todos hemos estado en el concesionario o muchos

comprando un coche o pensando en comprarlo y llega la pregunta siempre llega la pregunta cuántos kilómetros vas a hacer al año diez hamabost hogei mila porque depende depende de cuánto vayas a andar

y esa diferencia es la que te hace decantarte por uno o por otro

que se esté utilizando un impuesto medioambiental para rellenar

así que en este sentido nosotros ahora no podemos negarnos al debate que se propone desde el gobierno

desde la ministra rivera porque cada cosa tiene que ir a un sitio y si después tienen que venir diferentes empujes ayudas planes programas ya veremos pero esto es un intento de ordenación y ustedes lo que están intentando hacer es a través

discusión que hay acerca de cómo va a afectar y a quién va a afectar de repente aparecer como los amigos de los currelas de mercedes

entonces vamos a intentar poner cada cosa en su sitio no es el único problema y ni es el mayor

le voy a enseñar una foto no lo hago con mala intención se lo digo en serio

que ha tenido el porcentaje de ventas de diesel mientras ha estado la gaviota en la moncloa entiéndame la metáfora

y el ratio del diesel era del setenta por ciento ustedes se fueron esta primavera y el ratio del diesel era del treinta y cinco por ciento claro se puede decir que ustedes se han cargado la mitad del sector diesel verdad no usted va a bajar aquí y va a decir que no

y es cierto y sin embargo y sin hacer nada para ir en contra del diesel

eso quiere decir que el problema está en otro sitio el problema está no en que ahora a través del impuesto del diesel se vaya a estigmatizar a un sector

a sí mismo porque los problemas que tenía para pasar las cada vez exigentes normas medioambientales les ha llevado a dos cosas les ha llevado una a trampear legalmente y

cómo han trampeado legalmente y esto se está viendo ahora porque después del dieselgate están cambiado los protocolos de homologación por qué porque los protocolos de homologación antiguos no daban las emisiones reales sobre todo de óxidos de nitrógeno partículas y demás también de ce o dos que estaban emitiendo los diesel

que es que a pesar de estar con las normativas euro cinco euro seis y tener

resulta que las pruebas de conducción real nos están diciendo que los vehículos diesel están contaminando más mucho más de lo que están diciendo

les ha concedido una moratoria para que las empresas puedan aprobar

del protocolo wltp que es así por sus siglas en inglés

no está habiendo desde el gobierno una guerra contra el diesel

no sea usted catastrofista los problemas vienen de mucho más lejos los problemas tienen que ver con la dificultad de adaptarse a las normas medioambientales

el resto de la población que no está conduciendo un coche diesel también tiene derecho y también tiene que ver con otras cosas a medio plazo y no esto va a ir no solo para el diesel sino para la gasolina

están alimentándose de unos combustibles que son fósiles y que son finitos como todos sabemos

al gobierno vasco tenemos dos opciones tenemos la opción

de sacar pecho de tener una industria poderosa

nos da gran parte de ese superávit comercial que tenemos pues si tenemos

en la balanza comercial resulta que los cinco primeros sectores en exportación están relacionados con la movilidad

con lo cual si el sector sufre todos sabemos que la balanza comercial de araba bizkaia y gipuzkoa se va a resentir muchísimo

es que el sector el sector que está instalado que no quiere morir que quiere

no sé cómo decir que no quiere que se mueva nada porque ahora está en una posición cómoda y ha tenido a los gobiernos de lado

tenemos que junto con ellos por supuesto cambiar de dirección y lo estamos diciendo

que llega el debate del diesel la industria tose y enseguida metemos la cabeza

entendemos esto como una oportunidad de futuro o si no realmente en unos años vamos a tener un problema serio eskerrik asko otero jauna erantzuteko

no hay dos sin tres y ahí estamos en la tercera vez que un gobierno socialista un gobierno de euskadi hunde españa y en ello estamos cada mañana tenemos una sorpresa y ustedes son corresponsables sí corresponsables

porque si ustedes no votan no tendríamos ese gobierno cometiendo irresponsabilidades

por lo tanto son corresponsables de esto y de muchas más atrocidades que apuntan como esta mañana nos anunciaba la prensa por lo tanto en eso estamos

no amplió este impuesto en el dos mil doce se imaginan la que hubiesen montado todos ustedes con un gobierno del pp aumentando el impuesto al diesel en el dos mil doce en quiebra en quiebra se imaginan la que hubiesen montado ustedes tienen un discurso para todo

también del señor rajoy por no haber aumentado en el dos mil doce el impuesto era imposible hacerlo

pagando la juerga que habían montado el guateque que se montaron con las renovables ahí estábamos y más cosas por lo tanto señorías no sean cínicos estábamos saliendo del túnel y esto

y entonces ustedes lo que han hecho es cambiar de gobierno

se engordan engordan el bolsillo y el partido todo

por eso lo hacen y por eso les digo que son corresponsables porque de cada cosa ustedes sacan beneficio en esta situación

ahora sí ustedes no quieren un gobierno fuerte en españa

no se sienten no se ven pero ahora son importantes por eso mismo lo hacen ahí están porque señorías

el repartidor el taxista el comercial el agricultor claro que sí señor otero el currela claro

el currela se va a pagar y a costa del currela se paga el guateque del gobierno que ya veremos en qué acaba esta película porque claro señor otero

y para gasolina y para la electricidad qué utilizamos el uno coma tres por ciento de renovable

pero de qué estamos hablando o sea que estamos en la realidad que tenemos llegar a tener el veintidós por ciento de la nuclear o el veintitrés por ciento de

de carbón exacto luego tenemos los mix pero es que estos señores no han hecho nada

nada porque no quieren ese debate señorías no quieren el debate y ustedes tampoco les aprietan no están tranquilos

ahora no están tranquilos explíquenlo señorías en el país vasco

sí sí es españa y es el país vasco y voy a hablar de lo que nos afecta

este gobierno porque no tenemos iniciativa del gobierno

un plan renove lo puede hacer por qué no por qué no una enmienda de transacción que no dice nada nada

es imposible nosotros décimos que no se puede subir

lo que el gobierno y responsable estigmatizó el diesel

la aplicación del impuesto es el anuncio lo que hizo caer porque efectivamente señor otero venía cayendo el diesel tres cuatro por ciento cinco eso lo dice mercedes ustedes se van a cargar a mercedes y a petronor no también porque claro no lo sé qué va a pasar aquí claro que venía cayendo pero es que ha caído un veinte por ciento

pero fueron las palabras mal dichas mal anunciadas sin un análisis previo sin una información previa poniendo el foco en lo que debe ser que es el vehículo antiguo que hay que quitarlo y ustedes no han puesto una medida para quitar ese vehículo para que no contamine ustedes hablan de cambio climático de medidas para el cambio climático y no han puesto una medida que lo pueda hacer el gobierno

por qué no lo ponen ni un deber a este gobierno

en medidas para el cambio climático ya lo ha dicho la señora gorospe

ustedes lo han escrito pero le han dicho que no puede ser que no lo van a hacer por lo tanto

lo que han firmado y de lo que han puesto aquí a votación mire señorías el setenta por ciento de la subida de impuestos anunciada por el psoe y podemos

este gobierno nos hunde y ustedes son corresponsables y esto lleva un paso muy negativo para la sociedad y para las personas dice

qué hay detrás de la actividad económica amaitu mesedez sí brevemente

es urgente un plan renove lo podemos hacer en el país vasco y no veo que ustedes tengan ningún empeño repito irresponsabilidad del gobierno de españa que ustedes son corresponsables está hundiendo el sector y está teniendo efectos negativos

sí y voy a seguir mirando no solo en esto en todo
porque esto va en cascada eskerrik asko lópez de ocariz anderea eskerrik asko

tiene razón señora gorospe que efectivamente no es un nuevo impuesto y yo no creo que lo haya dicho así creo que he dicho modificación proyecto de modificación de impuesto

la idea que hemos intentado trasladar en nuestra enmienda y yo creo que hemos recogido en la enmienda transaccional eta estigmatizazioari buruz

kalean dabil iruzurrak egin dituztela y por eso por eso y porque el diesel tiene una situación anómala

desde el punto de vista de la fiscalidad es por lo que hay que tomar medidas

no podemos seguir pensando que bueno

se puede seguir indefinidamente así los nuevos motores diesel se ha referido antes la señora lópez de ocariz

van camino de ser un nuevo fraude van camino de ser un nuevo fraude no por el motor en sí sino por cómo se están utilizando leo dos noticias simplemente

los camiones llevan un pequeño aparato electrónico que sirve para trucar el ordenador de a bordo de camiones y furgonetas

que es el que permite que los nuevos motores diesel reduzcan un noventa por ciento sus emisiones

marzo de dos mil dieciocho la ertzaintza detecta un nuevo método de manipulación en el sistema que reduce los gases contaminantes en los camiones el problema no es del combustible el problema es de los motores

con las normativas con las estrictas normativas medioambientales de la unión europea y de estados unidos y en eso se reduce todo en eso se reduce todo por lo tanto

añadiría una cosa que también dijo la ministra una finalidad de transición energética va una cosa con la otra

los combustibles fósiles no van a durar indefinidamente son finitos son finitos

y a día de hoy fabricando vehículos de combustión interna tenemos una sostenibilidad limitada y sobre todo tenemos unas perceptivas de futuro que no voy a decir amenazadoras por mantener un poco ese rigor pero desde luego que sí

y ahora que la industria está en sus máximos porque no estamos hablando solo de que mercedes esté en sus máximos es que volkswagen de landaben también lo está

está a un ciento treinta y tres por ciento de su capacidad y sin embargo se está planteando despedir novecientos personas

el debate de la fiscalidad está agotado porque ya lo he dicho la señora rojo tenemos que cumplir con las obligaciones que nos marca europa y tenemos que hacerlo sin perjudicar a las personas de rentas más bajas y sobre todo tratando de que nuestra industria

con un plan que le permita hacer frente a los riesgos futuros que desde luego ya se empiezan a
percibir en el horizonte nada más eskerrik asko becerra jauna

gracias señora presidenta efectivamente hoy cuatro grupos parlamentarios que tenemos muchas diferencias cuando hablamos de energía y que muchas veces

dice mucho desde luego dice muy pocas barbaridades acerca de las que usted pretendía que este parlamento apoyará y efectivamente hoy usted

asistido al espectáculo de la desesperación de un partido que no entiende que hubo una moción de censura que terminó con un gobierno

mal y en lo que tiene que ver con energía aparte de que europa mandata y hay que cumplirlo aparte de que tenemos una apuesta clara por acabar con los combustibles fósiles aparte de que tenemos claro qué es lo que queremos para el futuro de la ecología aparte de todo esto

y es normal que ustedes no estén de acuerdo con nosotros en esto por lo tanto no nos sorprende

pero es que usted es capaz de hablarnos de las energías renovables teniendo en cuenta que ustedes hicieron el impuesto al sol

y que se arruinó en aquel momento ni les preocupaba los trabajadores ni les preocupaba las renovables ni les preocupaba nada le diré que el impuesto del diesel que anuncia la

es un impuesto progresista que desde luego aparte de que es un impuesto progresista

es un impuesto valiente pero un impuesto reclamado es un impuesto medido porque esto no es algo que se le ocurre a alguien y no hay informes como usted dice como si alguien se levantó una mañana y dijo vamos a poner el impuesto al diesel eso señora lópez de ocariz

hacer un trabajo con rigor una cosa es que usted no lo comparta en su derecho está y es legítimo pero lo que no puede usted venir aquí es a

efectivamente este impuesto nace de un ministerio concreto del ministerio de transición ecológica y de cambio climático solo por eso lleva implícito la defensa de la ecología la preocupación medioambiental y todo lo que esto supone pero en este caso me alegro de haber llegado al acuerdo alcanzado

por la generosidad que han mantenido en toda la negociación para ser capaces de llegar a este acuerdo

porque el partido socialista no tienen nada que ver con el partido popular en el futuro que se plantea en la energía y por tanto en fin que salieron del gobierno de españa como salieron y desde luego en fin no sean ustedes los valedores de todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores porque podemos otro día dedicar un debate a cada una de las medidas que han afectado a los trabajadores de este país por cierto mientras unos se enriquecían y otros acababan despedidos

ni yo ni usted ni seguramente el resto de compañeras y compañeros que estamos aquí porque yo creo que es algo que en esa caracterización de las personas pues es una característica que tenemos yo creo que por fortuna

con un poco de humildad también ustedes dicen que nosotros lo que queremos es un gobierno del estado débil en absoluto queremos un gobierno del estado débil no en absoluto porque a nosotros nos afecta también otra cosa es que nosotros aprovechemos todas las oportunidades que se nos puedan presentar en madrid y aquellos momentos de oportunidad aquellas ventanas

abrir para que podamos defender y pelear por lo que usted mil y una veces habrá oído de nuestras declaraciones que es

pero no lo hacemos solo ahora es que lo hicimos con ustedes con rajoy y en aquella época nosotros sufríamos este tipo de ataques y este tipo de debates por parte de otros grupos parlamentarios nosotros

apoyando y nosotros en realidad lo que estamos es apoyando las posibilidades que podamos tener de seguir adelante y de conseguir cosas que a nosotros nos parece según nuestro proyecto y

opinión que son buenas para euskadi antes decía usted que no habíamos hecho nada uno de los quince objetivos de país del gobierno vasco es la reducción de un veinte por ciento de los gases de efecto invernadero

ese es el objetivo para el dos mil veinte y a junio del dos mil dieciocho

invernadero era del veintiséis por ciento por lo tanto según eurostat por lo tanto algo debemos estar haciendo

no he podido responderle que qué mix energético teníamos

en la comisión de desarrollo económico cuando presentó el plan integral de movilidad y decía no es suficiente que sea eléctrico para que sea sostenible efectivamente decía ella depende del mix energético nuestro mix energético a día de hoy no es el más sostenible posible

tenemos que ir avanzando hacia uno más renovable a un mix energético de mayor energía renovable tenemos que cumplir y ella decía si cumplimos con los compromisos que hemos adquirido en parís y con la estrategia de cambio climático

yo creo que se está actuando con absoluta transparencia diciendo dónde podemos tener algunos puntos y puntos de mejora donde se tiene que ir trabajando y para eso pues tenemos que ir adoptando medidas yo no he dicho que no se pueda hacer con este impuesto

como podría ser un impuesto del tipo céntimo sanitario sino que todo lo que se recaude va a ir iría a un fondo a unos ingresos que servirían para financiar políticas públicas y servicios públicos distintos y también estos

considerable según parece ser la voluntad del gobierno y el acuerdo al que han llegado el sector tiene que ir cambiando

tiene que ir cambiando la dirección eta batzordean lehen aipatu dudan batzorde horretan ere

la automoción tiene que reconvertirse y hacer la transición

el propio clúster de automoción lo está haciendo está haciendo una labor importante es el sector privado quien lo está tomando decisiones muy importantes y lo está haciendo ya modificando sus procesos productivos adecuándose a los nuevos servicios vinculados a la movilidad sostenible

no solamente se han endurecido las normativas sino que también hay algunas ciudades que a la vista

del diesel en las zonas metropolitanas han dado problemas muy específicos y muy concretos de contaminación que además ha sido una contaminación muy grande como nos están diciendo los informes de la unión europea derivados del óxido nitrógeno derivados de las partículas pequeñas y demás

después de este abuso lo que ha pasado es que hay otros sectores ciudadanos que se han movilizado y que están poniendo barreras ese es realmente el problema que tiene el diesel y es el sitio el que tendrá que recuperar la confianza el propio sector

abandona el diesel suzuki abandona el diesel toyota abandona el diesel honda

la de démosle una oportunidad al diesel ezta eta esaten duzue

ongi etorri izaskun eta iñigo el uniforme que utiliza la compañía jaizkibel está compuesto por un pantalón y camisa blanca con una chaqueta negra y con un pañuelo de colores como

que simboliza la diversidad y la alegría y el respeto es un honor para mí ponerme hoy

este pañuelo símbolo de la lucha por la igualdad y la diversidad

en este pleno una iniciativa para apoyar el desarrollo del alarde mixto de irún

explícita que estas reciben porque consideramos que es también una vulneración de derechos humanos

en mil novecientos noventa y nueve la señora directora del instituto vasco de la mujer txaro arteaga anso decía en este parlamento que se debe garantizar el derecho de la mujeres que quieren participar en el alarde en igualdad de condiciones que los hombres por considerar que otra forma se vulnera el derecho fundamental de no discriminación por razón de sexo casi veinte años después oíamos a la directora

pasado ocho de septiembre ante los gritos e insultos que recibió la compañía jaizkibel al igual que muchas

algunas se le recibió con aplausos a la señora consejera

una pena que no esté hoy aquí y algún día me gustaría que me explicara cómo se puede apoyar y promover una escuela coeducativa e igualitaria y a la vez

la verdad es que me cuesta mucho entender que se puedan defender dos cosas esas dos cosas a la vez la señora landaida decía que los gritos contra jaizkibel no coinciden con el sentir mayoritario de la sociedad sobre la igualdad y recordaba que son muchas las localidades que con el apoyo de la ciudadanía están dando pasos importantes adaptando sus tradiciones para garantizar la participación igualitaria

y celebraciones el pasado ocho de septiembre recorrieron toda euskadi unas imágenes de hondarribia en las que un grupo numeroso de mujeres hombres adultas

eran fuertemente acosadas y hostigadas por participar en las fiestas de su pueblo una imagen que es muy negativa para el avance hacia la igualdad de mujeres

porque es el caldo de cultivo para mensajes discursos declaraciones y debates en los que se llega a poner en duda el derecho fundamental de las mujeres a participar plenamente de la vida política social económica y cultural de las mujeres un año más y ya son más de veinte

mixta las mujeres y hombres que desean participar en un alarde igualitario

con unos ayuntamientos que poco o nada facilitan su derecho en los alardes de irún

en bilbao la comparsa mamiki o en vitoria las neskas que se abren paso entre los blusas

están reclamando y poniendo en práctica desde hace más de veinte años

el avance es indiscutible pero queda mucho camino por recorrer y las imágenes del día ocho son una piedra en el camino un obstáculo para consolidar los valores de igualdad convivencia y respeto a los derechos humanos en euskadi

en una sola calle de la localidad vasca de forma muy gráfica impactante y ampliamente difundida en medios y redes se manifiesta la cara más cruda del sistema que obstaculiza a veces de forma invisible y otras veces de forma

euskadi debe tener y necesita mensajes claros firmes e igual de gráficos a favor de la igualdad se hace más que urgente

y las instituciones públicas deben de implicarse decididamente y de una vez por todas para normalizar la participación de las mujeres en el alarde de irún y en el de

en pie de igualdad el pasado ocho de marzo nos recordaba de la mano del movimiento

todos y digo todos los ámbitos de la vida para conseguir la igualdad real

en nuestras fiestas y es urgente que dediquemos todos nuestros esfuerzos a la lucha para garantizar todos los derechos

incluido el derecho a la participación en una fiesta porque solo mediante la participación igualitaria enriquecemos nuestras sociedades y las transformamos en más justas llevamos veintitrés años escuchando ruido en esa calle la calle mayor de apenas trescientos metros

llevan veintitrés años con empujones con pitadas

de mantener el rigor histórico porque como casi en todas las tradiciones esta también ha sufrido muchos cambios por ejemplo incluyendo a las cantineras uniformes así como las personas que lo integran

ser veraneantes o migrantes o simplemente amigos de alguien que tiene un amigo que desfila

se les prohíbe desfilar solo por ser mujeres nada más fíjense un dato cualquiera de los hombres que están aquí en este parlamento ahora mismo el año que viene el ocho de septiembre podrían desfilar

discriminatorio de hondarribia cualquiera de vosotros en cambio nosotras las mujeres que estamos hoy aquí no podríamos desfilar libremente

desde elkarrekin podemos creemos que ya son muchos años de ruidos de insultos de plásticos negros y también muchos años de piloto automático

a este pleno esta iniciativa una iniciativa sencilla y simbólica porque creemos que ya han pasado muchos años sin que se reconozca la injusticia que sufren las personas que desfilan en los alardes igualitarios en ese sentido entendemos que la representación

es importante pero insuficiente porque el mensaje urgente es imprescindible para las mujeres vascas y toda la ciudadanía debe ser que todo el gobierno vasco representado por sus máximas autoridades mujeres y hombres estén comprometidos

la igualdad y la convivencia con todos los derechos humanos en un lugar central en todos los lugares de euskadi es una pena que se acaba de ir el lehendakari

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a mostrar su apoyo sin fisuras a la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos

municipios de euskadi a través entre otras acciones de la participación de nuestra máxima autoridad el lehendakari en los próximos alardes de hondarribia e irún

en igualdad de oportunidades por eso decía antes que tener y necesita mensajes claros firmes

a favor de la igualdad y qué mejor que el lehendakari que es una pena que no esté ahora mismo sentado en su sitio escuchando esta iniciativa tan interesante el lehendakari de todas y de todos acudiendo al alarde igualitario dejando claro su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres a participar en las fiestas y nos dicen que si queremos negociar este punto

piloto automático que es lo que han estado haciendo durante todos estos años piloto

de emakunde y piloto automático me gustaría saber tanto

rojo como por la señora berasaluze que me digan cuál es el motivo por el que consideran que el señor lehendakari no tiene que ir a recibir al alarde en los días festivos por qué no quieren es por protección es porque no quieren que pase ese mal trago que pasamos las personas comprometidas con los alardes igualitarios

o porque realmente les importa poco lo que allí pasa quiero agradecer a la señora etxebarrieta

que esta iniciativa hubiese abarcado un poquito más y nada más que decir de momento que eskerrik asko y que me gustaría saber repito

cuál es el motivo por el que consideran que el señor lehendakari no tiene que acudir a recibir el ocho de septiembre a la compañía jaizkibel y el treinta de junio al alarde igualitario

consejeros parlamentarias y parlamentarios estamos un año más hablando de este tema

hemos podido constatar una vez más que ni entre los grupos hemos sido capaces de llegar

a un documento único quiero comentar un poco lo que han

que mire imaginarse que el ochenta y cinco por ciento de la población de dos municipios es machista o discriminatorio es algo difícil de creer porque estamos hablando del ochenta y cinco por ciento de unas ciudades que son modernas que son abiertas que son solidarias

pero además esa acusación de discriminatorio que usted mantiene aunque en el texto no viene es absolutamente injusta vamos a ver hay diferencia de pareceres sobre si la ley se cumple o no quienes fallan son los tribunales y los tribunales han fallado que ni el alarde tradicional de irún ni el alarde tradicional de hondarribia son discriminatorios luego me parece una absoluta injusticia seguir insultando a la mayoría de la población de irún y a la mayoría de la población de hondarribia

en qué sentido han fallado los tribunales pues en considerar que no es discriminatorio porque es una representación una representación como hay muchas

de toda la geografía europea pero por irnos más cerca se representan

se representa la pasión se representa la llegada por ejemplo de elcano a sevilla se han representado las representaciones como tales los tribunales han fallado que no son discriminatorios y también

que yo comprendo esa apelación a los sentimientos y las emociones pero me parece un poco

escuchar las de una propia parlamentaria todos hemos tenido nuestros principios aquí mire yo con la edad que tengo que soy la segunda más mayor de este parlamento

empezó la política con dieciocho años me imagino que también estaría temblando mujeres todos entonces por favor saquemos esto un poco del ámbito personal

hablemos de emociones colectivas pero no de las nuestras propias

no creo conveniente decirlo por el micrófono bueno vamos a ver

a la señora etxebarrieta decirle entonces estamos

ante unas fiestas que no son discriminatorias

porque lo han dicho los jueces y ya cuando lo dicen los jueces y se recurren a las distintas estancias

esa resolución o sea lo de discriminatorio paremos de insultar al ochenta y cinco por ciento de la población de irún y al ochenta y cinco por ciento de la población de hondarribia y respetemos que tiene el quince por ciento de la población de irún y el quince por ciento de la población de hondarribia de celebrar las fiestas de otra manera ustedes

de diversidad de diversidad y les vuelvo a decir lo que ya he dicho en dos comisiones ustedes han inventado

diversidad en la unanimidad qué más diversidad

pueda celebrar sus fiestas como quiera eso es verdaderamente diverso eso es verdaderamente enriquecedor

que hay que escuchar y que hay que hablar yo que también soy concejal de irún he hablado con las dos partes y saben el problema que tenemos

el alarde tiene ninguna pega desde el punto de vista normativo ni jurídico unos me dicen sí sí que si quiere la gente celebrar el alarde de otra forma que lo haga

pero otros me dicen no tu obligación es prohibir

y esa es la historia unos están dispuestos a que se celebren los alardes de formas distintas y otros lo que te piden es

un tipo de celebración del alarde y yo lo siento mucho pero como responsable política y que también he tenido responsabilidades de gobierno

arbitrariamente que se organice y celebre como quiera ya les digo una representación que me está acudiendo a la mente es esa que se ve un montón de señores como andrajosos saliendo de una nave en sevilla porque están representando

después de dar la vuelta al mundo son representaciones

sacan ustedes con mucha frecuencia que el alcalde y los concejales de algunos grupos

mire yo soy concejal de irún y me he comprometido en el pleno de irún en los medios de comunicación y lo vuelvo aquí a hacer

a que si los alardes mixtos o la compañía se relacionan con el ayuntamiento yo que soy concejal para todos recibiré los dos

como el alarde mixto de irún van al departamento de interior y le piden permiso para hacer una manifestación

cualquier charanga cualquier asociación lúdica y por supuesto el alarde tradicional van a su ayuntamiento le piden ocupación de vía pública

entregan toda la documentación que se exige que es exhaustiva para cualquiera tanto el alarde mixto de irún como la compañía jaizkibel se saltan todos esos trámites dan la espalda a sus ayuntamientos

van a la consejería de interior y piden permiso para una manifestación yo defiendo el derecho que tiene tanto el alarde mixto de irún

lo defenderé siempre y lo he hecho siempre y si se relacionan con el ayuntamiento si no le dan la espalda a sus ayuntamientos en irún

no faltaba más porque creo en su derecho a celebrar la fiesta

pero en el derecho en el que no creo es que alguien me imponga a mí prohibir una forma de celebrar las fiestas

sin ninguna causa jurídica o normativa lo siento por ahí no paso

mientras que el otro grupo me dicen que si quieren celebrar la fiesta perfecto que la celebren como quieran

esa es la situación por eso nosotros mantenemos nuestra enmienda una enmienda que pide el cumplimiento de la ley una enmienda que pide el derecho

de cómo celebrar una fiesta cada uno lo celebra como quiere y un último punto sobre el que hablaré en la siguiente intervención que es el derecho a que nadie sea insultado a que nadie sea herido en su dignidad a que nadie se vea vejado muchas gracias

gracias presidenta y buenos días otra vez a todos ustedes

en muchas ocasiones pero en honor a la verdad hay que decir que en esta ocasión

la probabilidad de acuerdo ha estado sobre la mesa y señora arana no solo poníamos un único punto como condición para llegar a un acuerdo solo había

y usted pregunta me gustaría que me respondiera el tema del lehendakari es que el partido socialista de euskadi no cree que el problema

alarde ni empiece ni acabe con el señor lehendakari con su presencia o no creemos que es un

pero nosotros entendemos que hay que atacar al fondo de lo que ha sucedido en irún y en hondarribia y compartiendo muchas de las cosas y otras no que se han dicho en esta tribuna y sobre todo porque

nunca y creo que lo pueden decir quienes han compartido conmigo muchos años en este parlamento yo nunca he utilizado lo que esta parlamentaria ha vivido en lo más personal

se lo que es que te insulten por otros temas y sé lo que es sentirse muy solo y por eso

nunca voy a apoyar un insulto nunca voy a apoyar ningún tipo de violencia y por eso el primer rechazo a lo que ha sucedido en torno a la compañía jaizkibel porque como bien sabe esa compañía

en voz de la portavoz de las juntas generales de gipuzkoa que es petri romero en este tema

y el rechazo a la violencia ojalá otros hubiéramos sentido ese apoyo en otros momentos y ahora el debate que hoy volvemos a tener en torno a la igualdad

los alardes de irún y hondarribia siempre forman parte de un análisis que debiera ser ya un tema pasado y en ese objetivo debiéramos involucrarnos todas las instituciones y no solo los ayuntamientos concernidos las dos iniciativas acumuladas aunque de una forma diferente

y preparando este tema el otro día leí el siguiente titular los alardes de irún y hondarribia así como cualquier tradición que encorsete discrimine o conculque derechos humanos deben virar hacia posiciones aceptadas por toda la comunidad implicada y por supuesto no puedo

las tradiciones no son algo inamovible no es algo que deba mantenerse sin atender a los nuevos tiempos deben adaptarse a la sociedad de hoy a las demandas de hoy y por supuesto a la legislación de la que nos hemos dotado porque la ley no es si interpretamos o no la ley o se cumple o se incumple

y debiéramos velar todos por su íntegro cumplimiento el final de la celebración de estos actos festivos culminarán en el protagonismo de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y ya no habrá conflicto

cuando hablamos de este asunto esto es lo que creo que ocurrirá y es por lo que creo que todos debiéramos trabajar este asunto ha sido debatido como he dicho hace unas semanas en las juntas generales de gipuzkoa

y quiero repetir las palabras que la señora romero en aquel momento decía y sobre las que no tenemos ninguna duda el partido socialista de euskadi condena y rechaza de forma contundente cualquier agresión porque no importa la razón porque nada justifica la violencia ni en este tema ni en ninguno lo sucedido este año como otros en la celebración de los alardes son un paso atrás en la lucha por la igualdad

de que mujeres quieran participar de la celebración de las fiestas de su municipio de la forma que consideren o deseen pueda ser motivo de ruptura de la convivencia de agresiones insultos o rechazos la convivencia es un objetivo irrenunciable para cualquier demócrata

que hay quien piensa diferente reconociendo su derecho a expresar sus ideas

de uno termina donde comienza la del otro y esto debiera ser un principio que no debiéramos olvidar y no olvidemos tampoco que las calles de un municipio son un espacio público que por definición son de todas y todos

por encima de otras y en el asunto que hoy nos ocupa las instituciones debemos trabajar para garantizar el reconocimiento y la plena participación de las mujeres

sin matices y sin peros para los socialistas vascos detrás de este debate está el compromiso ético

alguna duda el pse apoya el desfile de la compañía jaizkibel

esa igualdad que va más allá incluso de lo que reconoce un texto legal la igualdad que gana a las palabras para ser tangible en las calles de nuestros pueblos y ciudades

las diferentes formas de sentir y de vivir los ciudadanos son fundamentales para determinar el futuro de estas fiestas y como decía en el pleno de control la representante de eh bildu la señora uriarte es verdad que son una minoría quienes protagonizan

de forma igualitaria respetuosa y sin conflicto pero con que lo hiciera uno merecería la pena acabar con la discriminación porque el respeto a la tradición no debiera sin incompatible con la evolución de la sociedad lo que sucede en irún y el hondarribia cada año cuando llega la celebración de sus respectivos alardes

que sabemos que ya se ha puesto a trabajar en este asunto y por ir concluyendo con este tema esto requiere serenidad para poder afrontar un debate en el que cada una de las partes pueda plantear sus opiniones requiere una búsqueda de consensos porque es urgente e imprescindible que se trabaje con una posición pactada

requiere responsabilidad porque somos los responsables públicos los que debemos velar por el cumplimiento de la ley sin renunciar a nuestros valores de igualdad la igualdad efectiva y real debiera ser un objetivo por el que trabajar de forma conjunta independientemente de las siglas que representemos

a mayor igualdad mayor democracia la sociedad vasca del siglo veintiuno debiera caracterizarse por los valores que recogen la convivencia

estamos en unos tiempos en el que esto ya no debiera estar en debate todo bajo el paraguas que otorgan las leyes

ojalá el dos mil dieciocho haya sido el último año en el que un municipio vasco sea protagonista de imágenes gestos y pronunciamientos alejados de la igualdad del respeto

trabajará por ello desde el lugar que le corresponda por tanto en lo que tiene que ver con esta iniciativa cumplimiento de la ley defensa de la libertad y de la convivencia y por supuesto seguir defendiendo y trabajando

más allá de textos y de discursos para acabar siendo una realidad tangible es verdad que estamos en un debate en el que el tono ha bajado y yo creo que eso es de agradecer por parte

y a ver si es verdad que entre todos nos ponemos a trabajar para que esto termine y por concluir

el lehendakari había hecho un ofrecimiento que era un recibimiento a hacer una recepción que es algo que se aprobó en un punto concreto iniciativa que se debatió en juntas generales de gipuzkoa pero para el partido socialista de euskadi es mucho más importante trabajar porque la igualdad sea real que si el lehendakari va o no entendemos que la figura de emakunde representa al gobierno vasco en lo que tiene que ver con la igualdad aunque es verdad que si bajamos al debate señora arana probablemente señora arana

cuando se quiere consensuar se quiere consensuar era una enmienda que tenía muchos puntos y solo había uno en el que había un problema creo que después de haber escuchado la intervención de esta parlamentaria

ninguna duda sobre cuál es la defensa que mi partido hace de la igualdad y del compromiso ético que adquiere para el cumplimiento de la misma nada más muchas gracias

salatzen ditugula condenamos firmemente las actitudes que se vieron el día ocho en hondarribia

no tienen cabida en una sociedad democrática como la nuestra eta alardeetaz hitz egitera etorri gara berriro eta ez da lehen aldia

entendemos que la solución de verdad al conflicto debería de trabajarse

cauces para el entendimiento pero que de verdad la decisión de cómo se va a vivir esa fiesta cómo van a convivir esas diferentes maneras de sentir la fiesta porque no podemos ignorar que existen dos maneras diferentes de entenderlo y

hay que oír a todos e intentar que hablen porque me decían que los representantes de la compañía jaizkibel que están aquí que a lo mejor me dirán que no es cierto y los de betiko alardeak de hondarribia pues igual llevan seis o siete años que no se hablan

constituida en la diputación foral de gipuzkoa puede ser un instrumento válido no creo que

el sentarnos el compartir y ver cómo podemos encauzar esta cuestión diseñar un plan de acción en el que ese estudie cuáles son las razones de este conflicto cómo y por qué se ha trasmitido porque llevamos veinte años hablando de lo mismo y los motivos por los que dos décadas después está absolutamente enquistado que creo que es verdaderamente el problema

propuestas simplistas de soluciones simplistas porque con todo el respeto señora arana pero creo que el insistir tanto en la presencia del lehendakari

yo entiendo personalmente que poco aporta a poner en vías de solución esta cuestión creo que también es importante otra clave

hau ere gehiegi politizatua izan dela horregatik esaten nuen que las razones del origen del conflicto son importantes que sean analizadas

contribuyamos a rebajar la tensión en este conflicto que yo entiendo que está absolutamente politizado y que es responsabilidad de todos nosotros colaborar en abrir vías de diálogo con este objetivo

agua porque me calma me sigue calmando a ver por dónde empiezo por un lado nos encontramos

alcalde del psoe de la señora mendia que abre el ayuntamiento para que entremos las personas que queremos recibir al alarde igualitario y se marcha por la puerta de atrás para no tener que cruzarse con el alarde igualitario

callar mandar a otros representantes de su partido y piloto automático me gustaría saber qué tiene que decir la actual ministra de igualdad carmen calvo sobre esto no sé si se lo han contado y qué opina ella

el alcalde de irún en irún señoras y señores del psoe van a hacer algo más por lo que veo señor andueza no se ponga nervioso que no pasa nada por lo que veo en lo que

por el otro lado nos encontramos con la situación de desprecio y discriminación

por parte de la asociación privada que organiza el alarde tradicional y el ayuntamiento de hondarribia que mediante carteles como los lanzados el año pasado

erradicar alcalde por cierto señora berasaluze que hace caso omiso de las obligaciones contraídas en materia de defensa y promoción de la igualdad

la igualdad es un derecho fundamental con reconocimiento internacional que empieza en nuestras calles y pueblos normalizar la participación de las mujeres en todos los ámbitos requiere de un esfuerzo colectivo y de un compromiso social e institucional claro y definitivo

y el alcalde del señor urkullu que lamento nuevamente que no esté aquí escuchando este punto que le interpela tanto el alcalde del pnv

sino que además y esto nos parece muy grave dirige un ayuntamiento que carece de una persona técnica de igualdad y de un plan de igualdad y es este el compromiso del pnv con la igualdad

que no tienen plan de acoso machista que no tienen plan de acoso sobre las violencias sexuales ni machistas

situar a euskadi entre los primeros países europeos en el índice de igualdad de género y en la lucha contra la discriminación laboral muy bonito

ante un problema de machismo lejos nos vamos a quedar de ese objetivo que tiene el señor

el problema estructural señora rojo pasa por unas instituciones que rechazan la participación de las mujeres en sus fiestas ese es el problema estructural que existe

que no están haciendo su trabajo representar a todas y a todos

sería hacer un gesto simbólico de cara a la ciudadanía y a sus alcaldes de que la igualdad está por encima de todo señora juana

el concejal del pp hay un concejal del pp en hondarribi que va a la iglesia y al paso de la compañía jaizkibel saca un cartel que pone betiko alardea

porque me parece que es de suma importancia que el tribunal superior de justicia vasco falló a favor del alarde mixto alegando que en una celebración pública

discriminar por razones de género qué hizo entonces el alarde tradicional pues una serie de maniobras para conseguir privatizar el desfile y así esquivar las exigencias del tribunal superior de justicia vasco y como en gipuzkoa no pudieron formarse como asociación porque incumplían la ley

se establecen su base en navarra nadie está diciendo aquí que haya un alarde que no desfile nadie está diciendo que no desfile alguien

todos y todas en un alarde público e igualitario y que las mujeres que quieran participar en ese alarde lo puedan hacer libremente porque es su derecho

y demostrar su compromiso con la igualdad porque a otras fiestas sí va le vemos en el dos mil cuatro

muy interesante hace mira dos días después o antes del alarde en la vendimia la fiesta de la vendimia de la rioja alavesa

que no tiene ningún problema por qué no acudir a una fiesta en la que se está generando un problema y decir basta ya de machismo y discriminación

le planta cara al alcalde de hondarribi y le dice sí o sí

otro más dos días después del alarde de hondarribi visitando anoeta

que ir a mediar y a recibir a un alarde igualitario que está luchando por la igualdad

esto no es un problema de convivencia esto es un problema de discriminación porque lo único que se prohíbe es a las mujeres a participar en las fiestas libremente y punto

mota bateko babesa ezinbestekoak direla con la esperanza de que no necesitemos

o que vengan solo a disfrutar y a potear en la calle mayor de irún

empezando la señora etxebarrieta mire señora etxebarrieta en irún

en el año el dos de enero sea siempre el de la junta de mandos del alarde para organizar el alarde tradicional es decir el alarde tradicional

luego lo que sí querría decirle a esta cámara es lo siguiente

están pidiendo que se sienten a hablar mediación etcétera etcétera hay una parte hay un modo de participar las fiestas que se siente profundamente insultada por las instituciones y eso es así

entienden que se les llama machistas entienden que

claramente por una forma de celebrar el alarde entienden que ellos organizaron un alarde en el que desfilan unas sietecero sietequinientos personas es algo muy costoso y se hace todo con dinero

mientras que el alarde mixto recibe todo tipo de subvenciones todo tipo de ayudas todo tipo de la diputación foral no sé si de emakunde tendrá pero desde luego de la diputación foral de gipuzkoa seguro entonces

si quieren ustedes pasar por encima de las emociones y de los sentimientos

de irún y hondarribia pues adelante pero yo no lo voy a hacer ni nuestro grupo lo va a hacer al mismo tiempo que defendemos el derecho que tienen

es que eso es la pluralidad la expresión de todas las formas de sentir o ver una situación

de verdad un poco de pena ya me da porque es que se le nota en lo que dice

nosotros queremos lo mismo que usted queremos lo mismo que usted queremos un alarde público donde pueda participar

existe existe las personas que quieren participar en un alarde mixto lo pueden hacer existe lo que me parece que usted silencia es que lo que quiere también es que el otro no salga

y que aquí el gobierno lo que tiene que hacer es impedir que haya ninguna hostilidad me voy a referir ahora a irún rápidamente porque veo que se acaba el tiempo en veinte años la cohesión familiar y social se ha unido

y hay respeto y hay respeto y las gentes de las mismas cuadrillas unos participan en uno y otros participan en otro

pero una de las cosas que más contribuyó a pacificar el alarde de irún fue algo tan simple como los horarios es que vamos a ver el departamento de interior pone los horarios

en el municipio de irún lo que se hizo fue que saliera antes el tradicional se les adelantó la salida y que luego saliera el mixto y a la tarde al revés con lo cual no confluían en las aceras los

con que tan solo adelantaran media hora los alardes y se viera primero el tradicional

y se hiciera al revés a la tarde tendríamos el problema solucionado

y celebre la fiesta como quiera y eso es pluralidad y eso es pluralidad y respecto a lo de recibir yo

cualquier persona que se relacione con el ayuntamiento yo estaré allí para recibirles pero mientras el alarde tradicional pida permiso para hacer una manifestación igual que si lo hiciera yo que sé

no la tengo pero si esas personas a las muchas de las cuales les tengo cariño se relacionaran con el ayuntamiento

hay coordinación entre el partido socialista de gipuzkoa y el partido socialista obrero español y le diré una cosa que hacía mucho que no utilizaba cuando me dirigía alguien de podemos

para aportar esto con los hechos hablan por ellos mismos año dos mil doce gobernaba patxi lópez euskadi el primer premio que da emakunde

entregado por la señora idoia mendia esa que usted ha hablado queriendo decir no sé qué respecto al alcalde de irún se entrega el partido socialista de euskadi la primera vez que emakunde da un premio y sabe a quién se lo da sabe a quién a los alardes igualitarios de hondarribia e irún y eso lo hizo el partido socialista de euskadi y por cierto

del pse es alcalde de los ciudadanos de irún de los que le votan y de los que no para que quede claro segundo dato año dos mil catorce

a la compañía jaizkibel quiero decir que por sus hechos se le conocerá y para hablar de todo un poco la secretaria general de juventudes socialistas de euskadi

participa desde hace diez años en el alarde mixto de irún

lleva diez años vistiendo de txiribitera en el alarde de irún por lo tanto aquí

que hay una persona que sabe lo que pasa en irún porque nosotros no lo negamos y durante diez años se viste de txiribitera para pasear por las calles de su ciudad en el alarde mixto

y para continuar le diré creo que hay que ampliar un poco la vista cuando hablamos de unos partidos y de otros y creo que hay que ser justos a la historia de cada partido

hubiera podido sacar algunas conclusiones que veo que usted no ha querido porque yo he sacado una conclusión

de intentar buscar un consenso que estoy segura que acabaremos lográndolo estoy segura y hay una parte señora arana que ha imposibilitado el acuerdo agarrándose a un único punto que era el único punto de disenso y usted decía no es un problema de convivencia

he dicho que es un problema de discriminación que afecta a la convivencia de dos municipios y eso nos debiera también preocupar eh

en el día a día de lo que ocurre en esos municipios y en todos y no solo únicamente cuando venimos a hablar de un tema puntual y por intentar concluir con lo que he empezado cuando

entrega el premio a los dos alardes no lo hace

de forma textual por la directora de emakunde por la batalla

los medios pacíficos quiero decir la señora idoia mendia que es quien entrega el premio

y va por las calles de su ciudad no un día como digo durante diez

y la señora maría silvestre son todas del partido socialista de euskadi

por tanto señora arana creo que en temas de igualdad lecciones

señora arana ustedes tienen un problema han llegado a las instituciones y quieren que el mundo se paralice

en función de cuando podemos se sienta en un escaño pues mire esto no es así

lea las propuestas de igualdad que propone carmen calvo en nombre del partido socialista obrero español y que apoya a mi partido en eso

que parece que tan mal no le parece cuando hemos pactado un poco esta misma semana

porque esta parlamentaria que no es de irún y no es de hondarribia pero conoce lo que sucede porque me he preparado mucho el tema

reconoce que hay un problema que hay que solucionar reconoce que hay una ley que no es interpretable señora bengoechea que hay que cumplirse y trabajaremos

le digo a la portavoz del partido popular cuando decía que hay un ochenta y cinco por ciento que

ni el ochenta y cinco ni el noventa y tres es que no hay que pasar por encima de ningún porcentaje porque todos son ciudadanos en igualdad de condiciones con los mismos derechos y la necesidad de vivir en libertad y nos hemos dotado de una ley en euskadi

porque en ese momento estaba de contertulio que está para cumplirse por lo tanto al partido socialista de euskadi y al obrero español ni media lección de igualdad

que con veinte años menos paseaba por las calles de irún y desde luego nunca pensó

hay que vestirte de txilibitera en cada uno de las fiestas de su municipio eskerrik asko rojo

konponbide batera iristea y señora arana

a usted también del pnv le interesa casi todo menos la opinión que tiene de las cosas porque creo que no sé si no me ha escuchado o no me ha querido escuchar ha escuchado algo de lo que he dicho nada de lo que he dicho le vale le he dicho por qué creo que la presencia del lehendakari

y he dicho que con todo el respeto que él me merece posicionarse en una parte que entiendo lo de la necesidad de la visibilización que decía la señora etxebarrieta pero creo que la propuesta que nosotros hacíamos de que el lehendakari está dispuesto

en esta cuestión y aportar también desde su máxima responsabilidad en este país algo para que no volvamos a estar el año que viene otra vez hablando de esto aquí pues creo que era

la señora rojo la que ha insistido en algo que creo que es una propuesta de solución bastante simplista para un problema que entiendo que es mucho más complicado eskerrik asko

obligatorio de vejez y de jubilación corresponde a mujeres

ere pentsiodunak dira gehienak hirutik bi emakumeak datos que reflejan la realidad de miles de mujeres que trabajaban en negocios familiares pero nunca fueron dadas de alta solo se daban de alta ellos mujeres que no tuvieron acceso a sectores de empleo de calidad como

mujeres que han entrado y salido del mercado laboral para cuidar y

mujeres que sufrieron en muchos casos una expulsión del empleo remunerado que fueron condenadas a los cuidados por una concepción de lo que ellas también entendían que eran sus obligaciones

cuando habláramos de memoria histórica y creo que es una reflexión muy interesante que quería compartir con vosotras porque a diferencia de por ejemplo los sindicalistas represaliados las mujeres nunca han sido compensadas

también hay que decir que los recortes y las reformas que se han dado en los últimos años en los sistemas de pensiones han afectado de manera muy significativa a las mujeres

se produjo también la desaparición de la pensión y los mínimos compartidos que se reconoció con la aprobación de la ley de separación y divorcio que pasó en dos mil siete a ser una pensión de compensación y que dejó a miles de mujeres que no tenían esa compensación por parte de sus maridos sin pensión de jubilación

para el cómputo de la generación se aumenta en dos años

de esta opción en el dos mil doce se produce la supresión del convenio a cargo de la seguridad social para cuidados familiares y esto también deja un montón de mujeres fuera de sus posibilidades y trunca de alguna manera sus carreras de cotización

se rebaja al cincuenta por ciento y esto también afecta notablemente a las mujeres

que las jubilaciones anticipadas son cosas de hombre estas jubilaciones se dan sobre todo en sectores

y la tasa de actividad de las mujeres solteras mayores de sesenta años es mucho mayor

no pueden prejubilarse las mujeres porque tiene y tienen que seguir trabajando todos estos datos reflejan a las claras la precariedad de las mujeres pensionistas eta argi uzten du

honen erdian y toca reparar y compensar a estas mujeres que han sostenido la vida que sostienen la vida toca subvertir prioridades establecer nuevos equilibrios

un tuit que yayo herrero hizo a cuenta de las movilizaciones de pensionistas que decía que una sociedad decente es aquella que reconoce y se ocupa de sus mayores entierra su memoria y que no las condena a la perpetuidad y yo añadiría que una sociedad decente es aquella que reconoce el valor de los cuidados que se responsabiliza de los mismos
que los valora y que desde luego no condena a la precariedad ni a la oscuridad a las mujeres que han sostenido la vida eskerrik asko eskerrik asko kortajarena

bien al grupo socialista nos parece muy pertinente introducir la perspectiva de género también en lo relativo a las pensiones

que vienen padeciendo las mujeres se perpetua de forma insoportable cuando se llega al momento en la vida en el que según el artículo cincuenta de la constitución

de salud vivienda cultura y ocio voy a empezar con esa segunda cuestión la de la obligación pública que los socialistas defendemos que debe atenderse desde un sistema público de pensiones que es el primero que se debe garantizar su sostenibilidad entendemos no puede estar entre dicho

y no hacerlo depender como se ha hecho en los últimos seis años de que los ingresos se reduzcan

por eso mi grupo quiere aprovechar este debate para ratificarnos en el amplísimo acuerdo de esta cámara el pasado uno de marzo en el que apuntábamos las medidas que creemos que se deben acordar

que se revaloricen más las más bajas que se blinde su financiación para que las cotizaciones no se destinen a gastos

que se garanticen las cotizaciones con la recuperación de los derechos laborales anulados con la última reforma laboral y que se ligue la mejora económica

hemos empezado ese camino desde que se produjo el necesario cambio de gobierno de españa y se va a continuar si los partidos a los que pertenecemos quienes estamos aquí y propiciamos ese cambio nos ponemos de acuerdo en las cuentas para el próximo año ya se ha sentado una obligación pactada en su momento la progresiva mejora de esas pensiones que afecta sobre todo a las mujeres las más bajas y las de viudedad

porque para corregir de cara al futuro esa brecha de la que estamos hablando hoy hay que actuar desde la base desde la gran brecha que afecta a sus salarios y a las condiciones en las que pueden ejercer sus profesiones y para eso va a ser importantísima la subida del salario mínimo interprofesional imprescindibles las medidas que igualan las responsabilidades parentales

y van a ser determinantes las medidas que se proponen para dar la vuelta a los aspectos más lesivos de la última reforma laboral

y con podemos la verdad es que resulta insultante que haya hoy quien demonice una propuesta política con esa base presupuestaria es insultante que se nos llene la boca al hablar de igualdad y despreciar como se está haciendo la subida del salario mínimo interprofesional

es precisamente a quienes más riesgo para sus pensiones futuras los jóvenes y las mujeres es insultante que alguien que dice tener pretensiones de ser presidente de gobierno

pero en ese acuerdo político previo se ponen las bases para que precisamente corrijamos esa brecha desde su origen

he comenzado reiterando nuestra defensa del derecho y la necesidad de contar con un sistema público de pensiones

que garantice en cada hogar también de las pensiones pensionistas la atención

como hemos explicado en debates anteriores el sistema público de pensiones es un derecho reconocido por la constitución y una necesidad en un país que se quiere definir como estado social el sistema público de protección social es un derecho que hemos conquistado sabiendo desarrollar nuestro autogobierno que los socialistas queremos que quede reconocido en el futuro estatuto y una necesidad que como la vasca tiene la firme voluntad de avanzar de forma cohesionada

hemos empezado por lo que está en nuestra mano en lo referido a salarios y condiciones laborales hay ya un plan de familias orientado a la equiparación de los permisos de paternidad y hay también un compromiso

aborden la discriminación de las mujeres esos ingresos laborales se está trabajando esta propuesta con medidas tasadas y evaluables algunas están en manos de las administraciones públicas

y creemos que la mesa de diálogo social donde están el gobierno y los agentes sociales sería un marco adecuado para asentar las bases de ese objetivo que todos décimos compartir por tanto de nuevo hacemos un llamamiento para que todos los agentes todos acudan a ese foro cuando se tengan que abordar las medidas que se anunciarán en unas semanas y también queremos reiterar nuestro llamamiento al consenso

eh bildu ha apuntado a esa mejora en su planteamiento inicial de cara a los presupuestos de nuestra comunidad autónoma

a la mejora de la calidad del empleo y a la rgi como cuestiones sobre las que podría favorecer esas cuentas no vamos a hacer ese debate hoy menos cuando ni siquiera está

pero efectivamente de esto hablaremos sobretodo porque ya tenemos propuestas encima de la mesa

de que alguien esté tentado de pensiones subsidiarias nosotros queremos hacer un debate de derechos no de ayudas y la rgi es un derecho sí pero es el derecho de quienes no tienen ingresos suficientes para subsistir y el objetivo de ese derecho por lo menos para los socialistas

que los trabajadores y los pensionistas tengan ingresos suficientes para atender todas sus necesidades vitales

en cualquier caso compartimos objetivos y creemos que tenemos que explorar todas las posibilidades de nuestro autogobierno para

para paliar el medicamentazo al que se ha empezado a poner coto con el nuevo gobierno

para quienes como ocurre con muchos pensionistas por distintas razones no acceden a las ayudas de emergencia social

por tanto hemos estado actuando no hemos parado de atender al colectivo de pensionistas

no paramos de defender un sistema público que lo haga posible y creemos que además es necesario este estudio específico

el grupo socialista quiere romper con esto ese bucle porque no estamos condenados a una desigualdad infinita

que firmamos los partidos que formamos parte del gobierno y por tanto nos felicitamos por el acuerdo es verdad que se habla mucho de las pensiones y más en estos últimos años

pero también es verdad que la situación de las mujeres también en las pensiones es algo que merece una especial atención por tanto felicitarnos del acuerdo y nada más muchas gracias

la situación de las mujeres pensionistas vascas y que nos lleva también a abordar

de género y como es el tema de las pensiones cuando hablamos de la brecha de género nos referimos a múltiples cuestiones en las que las mujeres

hablamos del mayor número de horas que las mujeres dedicamos al cuidado de la familia al hogar a las labores del hogar al cuidado de la familia

personas dependientes también hablamos de mayores tasas de temporalidad y parcialidad

parcial están ocupados por mujeres también hablamos del desfase en la remuneración de las mujeres en ese sentido quiero también aprovechar la ocasión para recordar que las mujeres que nos dedicamos a la cuestión pública y que estamos en este parlamento pues en ese sentido somos unas privilegiadas en relación o privilegiadas es

otras mujeres que trabajan en el ámbito privado pero quiero decir que la situación de desigualdad no se da a las mujeres que trabajamos en el ámbito público pero quería hacer referencia a ese desfase en la remuneración que cobran

como también la brecha salarial se dispara con la maternidad y en este sentido

en la mesa de brecha salarial hace pocos meses hablaba de la media anual de la ganancia de un trabajador en euskadi que se sitúa en veintisiete mil quinientos setenta y uno euros y que en los hombres en treinta y uno mil ochenta y nueve euros y en las mujeres veintitrés mil quinientos treinta y siete euros por lo tanto hay una diferencia

y sin duda esa diferencia salarial de las mujeres a lo largo de la vida laboral condiciona

del futuro por eso desde el partido popular del país vasco aplaudimos medidas medidas de justicia como las que se han puesto en marcha por parte del partido

un complemento de maternidad recogido en la ley cuarenta y ocho barra dos mil quince de veintinueve de octubre que se aplicó ya con efectos el uno de enero de dos mil dieciséis

que habían sido madres todos y creo que se ha dicho aquí también por la

que las carreras laborales de las mujeres son más cortas y las pensiones por lo tanto son más

que el complemento arbitrado y puesto en marcha por el gobierno del partido popular

fue una cuestión de justicia en relación a la brecha salarial que también en materia de pensiones tenemos las mujeres se estima además que este complemento de maternidad en el año dos mil diecinueve lo cobren quinientos en toda la geografía española lo cual creo que es un dato enormemente positivo aquí decía la señora kortajarena que las mujeres han salido y entrado del mercado laboral que han dejado de trabajar y creo que esta medida es una medida positiva como digo para

injusticias con las mujeres pensionistas y sobre todo con aquellas mujeres que han tenido que dejar su carrera laboral entrar y salir del mercado por atender a sus hijos y a las cuestiones familiares también cuando hablamos de la situación de las mujeres pensionistas tenemos que hablar sin duda de pensiones

elemento esencial de cohesión y solidaridad entre ciudadanos y estos valores se han construido por las aportaciones de muchas generaciones por eso décimos y nos gusta decir en el partido popular y yo lo quiero reivindicar otra vez desde esta tribuna

hablamos desde luego de una cuestión que afecta al conjunto de la población las pensiones nos interesa a todos a aquellas personas que hoy son pensionistas y que están preocupadas y por si van a seguir cobrando su pensión a aquellos que pretendemos serlo en el futuro por lo tanto hablar de pensiones es hablar de preservar nuestro estado de bienestar y desde luego creemos que estos debates hay que abordarlos desde la serenidad desde el rigor desde el consenso sin intentos de patrimonializar un debate que como digo a todos es una cuestión de estado afecta a nuestra convivencia a la solidaridad entre todos intergeneracional y por eso como decía es una cuestión que nos afecta a todos y por eso cualquier gobierno responsable tiene que garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones tiene que hacer viable el sistema y eso se hace con decisiones

que hagan que el sistema sea justo sostenible solidario equitativo y desde luego la solución

que garantiza la sostenibilidad y la viabilidad del sistema público de pensiones es generar empleo señorías porque si aumenta el empleo aumentan los contingentes

de hoy y del mañana es la creación de empleo cuanto más y mejor empleo y mejores pensiones quiero recordar en este sentido cómo el gobierno del partido popular dio vuelta a una situación especialmente crítica cómo en el año dos mil once

entra en el gobierno ganando unas elecciones por mayoría absoluta por cada

de la seguridad social cuando mariano rajoy deja el gobierno por un pacto entre distintos partidos para quitar al presidente legítimamente elegido por los ciudadanos

por cada nuevo cotizante se generaban seis empleos esta es la situación señorías en seis el gobierno del partido popular con decisiones responsables con decisiones

consiguió revertir una situación especialmente crítica y garantizar con reformar concretas las pensiones

futuro quiero recordar que en relación a lo que he dicho la mejor garantía para sostener un sistema público de pensiones es crear empleo y en ese sentido tengo que recordar que los años dos mil quince dos mil dieciséis dos mil diecisiete con el gobierno del partido popular con el gobierno de mariano rajoy

cada año esta es la situación por lo tanto creo que también es justo reivindicar

para garantizar nuestra estado de bienestar y en este caso el sistema público de pensiones

y dicho todo esto a lo largo de esta

que tienen incidencia directa y que tienen que ver muy directamente con esta iniciativa que nos ha traído hoy bildu que es el tema de la brecha de género con las distintas situaciones de desigualdad padecemos las mujeres y en ese sentido la situación de las mujeres pensionistas vascas pero también quiero reivindicar lo que hay que hacer y cuáles son las recetas

la valentía la convicción y el empeño de querer llevarlas a cabo

a favor del planteamiento inicial de la iniciativa presentada por eh bildu

emakunde va a hacer un estudio de la situación socioeconómica de las mujeres pensionistas a lo largo del dos mil diecinueve esperemos que también el gobierno sea diligente

a esta cámara para que podamos conocer la situación de estas mujeres y sobre todo también apelar en este punto a la responsabilidad de todos los partidos para

precisamente para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

desde el elkarrekin podemos entendemos que esta iniciativa es otro pasito más para

y puede contribuir a que se tomen medidas para intervenir sobre situaciones que estaban hasta hace poco

es una oportunidad de poner un granito de arena para mejorar la vida de las mujeres y reconocer su contribución anónima y persistente a nuestra sociedad celebramos el acuerdo que

las personas mayores son uno de los principales grupos de población en euskadi debido entre otras cosas al aumento de la esperanza de vida actualmente casi un veinte por ciento de las personas que viven en euskadi tienen más de sesenta y cinco años

porcentaje subirá previsiblemente los próximos años se prevé que en dos mil cuarenta

pueda rozar el tercio del censo total en esta ocasión

ser mujeres y mayores se constituye en dos fuentes de desigualdad en una sociedad todavía patriarcal son factores que nos colocan en situación de vulnerabilidad o alta vulnerabilidad

otro como clase raza origen orientación sexual o identidad de género los riesgos de ser excluidas se potencian aún más las mujeres mayores tienen vidas cotidianas que son el resultado de acumular todas las desigualdades que han experimentado a lo largo de toda su vida las diferencias que se producen en mujeres

mayores tienen que ver con sus historias de vida con el status que han adquirido con sus experiencias vividas

con un porcentaje elevado de jornadas reducidas contratos a tiempo parcial

peor pagados la precariedad del sector de los cuidados un sector fuertemente feminizado etcétera etcétera todo esto se va acumulando y superponiendo y va dejando huellas y se termina manifestando de forma alarmante por ejemplo en la cuantía de las pensiones como ya hemos hablado aquí en el último

el octavo informe perdón anual sobre el riesgo de la pobreza y exclusión hay un dato preocupante que también

casi todas son mujeres las pensiones de viudedad y que el veintisiete coma cinco por ciento tienen un importe inferior al umbral de la pobreza y un cinco por ciento de estas

del umbral de la pobreza severa un dato que es realmente

sobre esa realidad para poner en marcha medidas y mejorar la vida de las mujeres mayores pero no solo en los ingresos económicos se hacen

hoy día cuando están formalmente jubiladas

meter en la palabra trabajo solo aquello que pasa por el mercado y es remunerado ha sido una trampa para la mujeres porque ha quedado totalmente todo eso que se hace para sostener la vida que son los cuidados las tareas del hogar la educación y

el cuidado de las personas dependientes etcétera etcétera todo eso es trabajo y es imprescindible para sostener el sistema cualquier sistema las mujeres mayores de hoy han realizado toda su vida ese trabajo de forma totalmente y además empezaron a hacerlo en un tiempo en el que ni siquiera se conocía o no se difundía

visión parcial y miope de la realidad que proponen las teorías económicas tradicionales

empezaron a hacerlo en ese tiempo en el que las mujeres tenían como profesión sus labores hoy en día las mujeres mayores continúan siendo una pieza clave en el sostenimiento de la vida y de la reproducción social porque ellas

casi invisibles para las estadísticas y los grandes planes y que son un pilar imprescindibles en las familias con niños niñas y adolescentes

conciliación horarios escolares laborales desarrollo económico tenemos que recordar que sin ellas no son posibles porque sin ellas el mundo estoy segura que se pararía la falta de políticas universales de cuidados las carencias de las políticas de salud o educación son en gran medida resueltas y cubiertas por ellas

en su salud en la forma y el tiempo que dedican o mejor dicho que no dedican al autocuidado ellas que son expertas en cuidados y por eso y por todo eso es necesario que se impulse este estudio un estudio que fije la atención en aspectos económicos y también en todo lo que compone la trayectoria de vida de las mujeres mayores

su presente un estudio que analice las trayectorias laborales de las mujeres mayores en el trabajo que considera productivo y también que ponga lupa en todo el trabajo que no se considera productivo porque todavía en la actualidad hay quien se resiste a tener en cuenta que sin los cuidados no hay un sistema que funcione absolutamente imposible una sociedad solidaria como la vasca garantiza protección y bienestar a toda la ciudadanía y siempre teniendo muy en cuenta las situaciones que pueden generar mayor vulnerabilidad esperamos y deseamos que este estudio y el plan de medidas sean útiles para mejorar sus vidas

mayores en el pasado y en el presente a esta sociedad besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana

ha habido un momento en el que creía que estábamos en otro lugar que no era el parlamento vasco y en otro momento que no era este actual y entonces sí que me gustaría

qué es lo que hemos acordado hoy aquí que es lo importante y son que por unanimidad vamos a aprobar

y un plan integral para ayudar las mujeres pensionistas en euskadi en mi primera intervención en euskera que no quería entrar en el debate de lo que son las pensiones porque creía que no era el propósito de la proposición original y así me lo ha corroborado la señora kortajarena por tanto sí que me gustaría darle el valor al acuerdo que hemos adoptado hoy que es importante y
es ese dos planes específicos elaborar u diagnóstico y un plan integral para mejorar la situación de las mujeres pensionistas aquí en euskadi eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

es que en muchas ocasiones traemos debates que competencialmente

que afectan a mujeres vascas y sin duda yo quiero poner y volver a poner en valor las decisiones valientes del gobierno del partido popular del gobierno de mariano rajoy

de pensiones esas decisiones que han llevado a que en el año dos mil diecisiete por primera vez

de los gastos esas decisiones que nos ponen en evidencia las dos situaciones la situación que se encuentra el gobierno del partido popular en el año dos mil once en

se perdían tres cotizantes y cuando el señor mariano rajoy en una

ustedes una semana después de haber aprobado los presupuestos y de garantizar la estabilidad

se generaban seis empleos por cada nuevo

recordar la situación que se encuentra el gobierno del partido popular en el año dos mil once cuando llega al gobierno al que llega por mayoría absoluta

millónes de euros con unas pensiones congeladas que se tuvieron que garantizar con un gobierno del partido popular y con decisiones también que desde luego garantizaban la sostenibilidad de las pensiones todavía nos queda por saber la respuesta de por qué el gobierno del partido socialista

al fondo de reserva en el año dos mil ocho y dos mil nueve excedentes que tenía que haber destinado al fondo de reserva y que se destinaron a otras cuestiones

rojo bueno veremos cuáles son las cuentas para el próximo

del gobierno del partido socialista en este caso con pedro sánchez a la cabeza nos explicara cómo se va a pagar esa factura y

de esas hipotecas adquiridas por el señor sánchez para ser

del gobierno y la denostada reforma laboral a la que usted ha hecho referencia en su primera intervención ha posibilitado

veremos como acaba el dos mil dieciocho lo que sí que tengo que poner de manifiesto y recordarle señora rojo es que por primera vez

de crecimiento de españa para el próximo año en una décima y eso ha sido a raíz de que el partido socialista
y el señor sánchez ha llegado a la presidencia del gobierno eskerrik asko